no hay otra posibilidad de hacerla de otra manera egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

lo reiteramos la semana pasada y hoy volvemos a insistir porque

en la agenda política y de este parlamento y vamos a seguir trabajando para que así sea la desigualdad y las violencias tienen relación invertir en políticas de igualdad es invertir en la erradicación de las violencias machistas invertir para erradicar las violencias machistas es invertir

y esta a su vez sostiene la desigualdad y la discriminación porque cuando tocan a una nos tocan a todas cada agresión

mujer si te sales de los mandatos puedes ser agredida aclarado esto y quería hacerlo porque la semana pasada me pareció que no

porqué es importante abolir la desigualdad para

machistas decíamos en la interpelación que da lugar a esta moción que hemos tenido conocimiento de la situación de la administración de justicia en relación a las violencias machistas las denuncias aumentan según el consejo general del poder judicial en euskadi en el primer trimestre del año crecieron un ocho coma uno por ciento las denuncias por violencia machista de la pareja o expareja en datos publicados esta misma semana el poder judicial afirma que sigue en aumento durante el mismo

once coma cuatro denunciaron ser víctimas de violencia por parte de pareja o expareja mientras que actualmente asciende a once coma cincuenta y ocho por ciento

graves muy graves son solo una mínima parte del fenómeno de las violencias machistas ya que el poder judicial solo considera violencia de género la que se ejerce por parte de pareja o expareja y quedan fuera de esta estadística como todas sabemos invisibles todas las demás violencias que día a día sufrimos las mujeres

contra la libertad sexual han aumentado un cuarenta y tres coma catorce por ciento

con la entrada en vigor de la ley orgánica uno barra dos mil quince y ley orgánica siete barra dos mil quince se ha producido un incremento de las diligencias previas y procedimientos abreviados el volumen de trabajo que debe absorber la administración de justicia aumenta y la carga de trabajo supera los medios disponibles hay un acuerdo generalizado entre agentes sociales defensoras y también expresado por agentes judiciales en relación a que los juzgados los medios y la especialización son insuficientes para dar respuesta adecuada a las víctimas

de denuncias también mugarik gabe en su comparecencia en la comisión de trabajo y justicia por el informe feminicidio en euskadi y navarra dos mil diez dos mil quince nos hablaron de estas deficiencias y que

y sin embargo no hemos visto ningún gesto claro por parte del gobierno vasco que nos haga creer que se van a redoblar esfuerzos a través de más recursos y nuevas medidas

que tienen como principal consecuencia que las situaciones no puedan ser atendidas con la dedicación y el debido tiempo esto

revictimización y de que los procedimientos se realicen de forma no adecuada la sobrecarga tiene también consecuencias en las condiciones edilicias

existe saturación los espacios son escasos y están sobreutilizados lo que conlleva a situaciones no adecuadas según los estándares y recomendaciones internacionales

víctima y denunciado o entre este y familiares de la víctima o cruzarse en los pasillos acceso y lugares de paso

a niños y niñas de momentos tensos y de la escucha de testimonios que tienen un marcado contenido violento y una gran carga emocional

ya señalaba como preocupante la atención que reciben en nuestros juzgados los niños y niñas

que comparecen en ellos ya sean en calidad de víctimas o de testigos y por si fuera poco se ha detectado la necesidad de mejorar la especialización para abordar los procedimientos de violencias machistas tanto en los juzgados especializados como en toda la administración de justicia

la justicia cuando es ciega el género no es justicia los estereotipos y perjuicios atraviesan todos los ámbitos de la sociedad incluida la justicia

a esta de las mujeres la aplicación de prejuicios

esta situación de la administración de justicia debe preocuparnos y ocuparnos a todas y como es obvio muy especialmente al departamento de trabajo y justicia

marcha medidas para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres las niñas y los niños y adolescentes víctimas de violencias machistas y actualmente no se está haciendo bien con esta iniciativa elkarrekin podemos quiere impulsar medidas para contribuir a que el acceso a la justicia de las víctimas de violencias machistas sea real efectivo con garantías de no repetición y sin riesgo de revictimización hemos llegado a un acuerdo y lo celebramos consideramos que es un gesto mínimo urgente y necesario a través de este acuerdo instamos al gobierno vasco a aplicar de forma efectiva y real el principio de igualdad y no discriminación

de justicia del departamento de trabajo y justicia también a realizar como establece la ley cuatro barra dos mil cinco de dieciocho de febrero

periódicamente la evaluación de la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la comunidad autónoma de euskadi en materia de violencia contra las mujeres

entidades a elaborar un plan de implementación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas

en el trabajo con violencias machistas y en la administración de justicia así como los colegios profesionales de abogacía y procuraduría

al píe de este acuerdo que hemos alcanzado sobre los informes la ley cuatro barra dos mil cinco

establece que se realizará periódicamente la evolución de la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la comunidad autónoma de euskadi en materia de violencia contra las mujeres

que diez años después por fin se ha debido de actualizar esta evaluación

y desconocemos el motivo y nos parece una falta absoluta de transparencia nos gustaría saber cuándo se va a hacer público ese informe porque tenemos constancia de que existe

efectivamente se presente ese plan para dar solución a este problema para llegar a este acuerdo que consideramos tan importante hemos tenido que renunciar a marcar un plazo para la presentación del plan no entendemos la negativa a marcar esos plazos cuando la propia consejera de trabajo y justicia el tres de marzo daba respuesta escrita a una pregunta en la que afirmaba que se estaban tomando medidas para mejorar

a la atención de cito textual mujeres víctimas de violencia contra la mujer y entendemos que se están tomando medidas tendrán plazos para realizarlas en nuestra interpelación del diez de junio de forma más bien dubitativa y difusa también mencionó algunas medidas por qué la negativa a marcar plazos si ya existen un plan es tan simple

las medidas que se están tomando nos surgen dudas hay realmente un plan

son medidas puntuales y aisladas nos gustaría saber qué medidas y qué plan se tiene para poder abordar todo esto

para que realmente salga a la luz ese plan de trabajo y también vamos a trabajar e insistir para que el plan tenga asignación presupuestaria porque ningún plan si no está

por una asignación presupuestaria pues no se puede llevar a cabo y hablando de planes comprendan que hagamos un seguimiento y control exhaustivo al departamento de trabajo y justicia ya que hemos hecho una solicitud de información a todos los departamentos con el objetivo de conocer

para explicar que por esto por aquello por lo otro y por lo de más allá a un año de asumir hoy por hoy están sin un plan de igualdad no nos parece de recibo

sobre el pacto de estado de violencia de género lo hemos incluido por petición del pp pero debemos decir que es un pacto cojo y voy a decir

es cojo porque las medidas no tienen garantías económicas temporales ni legislativa para ser ejecutadas

de mil millónes a repartir entre todas las administraciones del estado a cinco ejercicios económicos pero de momento no hay nada por parte del gobierno ni tan siquiera el compromiso

o finalidad de las partidas presupuestarias por eso nos abstuvimos

si no garantizamos la prevención difícilmente vamos a

abordarlo no se permite la participación de las mujeres y colectivos feministas como lo hacen en otros organismos

impulsoras de esta defensa y de esta reclamación yo creo que difícilmente podemos llegar a acuerdos que sean totalmente realistas

de ley orgánica uno barra dos mil cuatro de medidas de protección integral contra la violencia de género necesitamos un marco de violencias machistas

queremos un pacto útil un pacto

no lo es repito que muchísimas gracias a todas por el esfuerzo llegar a este acuerdo

a seguir muy de cerca lo que se hace y lo que se deja de hacer y si vemos que no hay una respuesta clara volveremos a traer a esta cámara de nuevo
este debate seguiremos trabajando y seguiremos insistiendo eskerrik asko eskerrik asko arana

gracias presidenta lehendakari consejeros señorías buenos días a todos señora arana efectivamente con que existiera una sola víctima

de cualquier tipo de violencia por estos delitos sería suficiente para activar todos los mecanismos que desde hace años están poniendo en marcha para cambiar el sistema

de nuestra prensa de nuestra actividad judicial y de nuestra vida diaria en la sociedad

pero el problema es que efectivamente no solamente existe esa víctima sino que existen muchas más y que el problema que arrastramos es un programa de gran calado y un

del gobierno vasco y a todas las instituciones del estado y por eso precisamente yo sí que estoy a favor y por eso mi grupo

los grupos políticos hayan podido hacer sus aportaciones y haya podido salir adelante porque entiendo que va a ser una herramienta fundamental para erradicar este problema que tiene la sociedad

crítica de la situación actual del departamento de justicia

existen fallos hay deficiencias hay ineficacias y hay cosas que se pueden mejorar la visita

el entrevistarse con los profesionales que trabajan ahí le darían una visión completamente distinta de la que usted nos ha querido trasladar hoy aquí que me parece por otra parte una falta de respeto tanto a la realidad existente como a todos los cientos de profesiones que en la comunidad autónoma del país vasco trabajan

en este reto tan importante desde los magistrados abogados

miembros de los equipos psicosociales de los juzgados y tribunales y otras muchas administraciones que colaboran paralelamente con la administración de justicia para erradicar estas violencias

con un gran esfuerzo con medios suficientes aunque perfectamente ampliables y consiguiendo

se sientan acompañadas por eso le digo que poner en marcha iniciativas de este tipo tan alarmantes de que hay que hacer

pues no me parece adecuado a la realidad porque ese trabajo se viene haciendo desde hace muchos años de la misma manera que no podemos decir que el pacto de estado contra la violencia de género se ha puesto en marcha en unos pocos meses y que se ha aprobado

sin ningún sustento anterior porque efectivamente venía apoyándose en el trabajo y en la evaluación de todos los planes que durante muchos años

de distintas administraciones tanto el gobierno del estado como los gobiernos de las comunidades autónomas y los gobiernos locales la evolución de todos esos planes permite que salga adelante este pacto de estado que usted dice que no tiene medidas concretas y yo le digo que sí léaselo por favor propone modificar artículos concretos de la ley del dos mil cuatro propone modificar artículos concretos exactamente en qué párrafo de la ley de enjuiciamiento criminal del vigente código penal sí efectivamente cuenta con partidas presupuestarias por importe de mil millónes de euros para los próximos cuatro años

de muchas administraciones y de todos los grupos políticos menos el suyo para ponerse en marcha señora arana usted sube a la tribuna o desde el escaño en este caso

y es verdad que cuando se llega a un acuerdo todos en esos acuerdos pues tenemos que perder parte de nuestros intereses para consensuar una idea común

de la situación actual es contradictoria con el acuerdo al que hemos llegado absolutamente contradictoria

y usted se lee el acuerdo que nos ha propuesto y que todos hemos firmado nos habla de seguir aplicando luego se aplica

seguir contando luego se cuenta y con poner en marcha las conclusiones de los planes de evaluación que ya se han hecho conclusiones que están en marcha y que los propios planes ordena que se deben implementar por lo tanto señora arana nada nuevo

han querido ustedes aportar al plan que se aprobó en julio en madrid al plan de estado al acuerdo de estado de todos los grupos políticos menos el suyo quizá
porque lo que quieren es una iniciativa que haga mucho ruido pero realmente no tienen grandes ideas que aportar a esta situación muchas gracias eskerrik asko

eta epaile batekin hitz egin ahal izateko y eso no se puede consentir no se puede decir que estamos por ayudar a las personas a las mujeres a los niños a las niñas a los jóvenes y a las jóvenes

violencia machista o que sufren otro tipo de violencia y tenerles doce horas esperando en un pasillo de un juzgado de violencia y eso pasa eso pasa y pasa muchas veces pero es que no solamente pasa eso

que denuncian y los denunciados entran por la misma puerta se sientan en el mismo sitio las abogadas no tenemos un espacio físico para poder entrevistarnos con nuestras clientas o con nuestros clientes

no pueden contarnos las cosas con tranquilidad y esto es lo que hay

desde dos realidades que son las que nos tienen que plantear las medidas una es que la violencia machista constituye un problema grave importante y estructural

y ello exige por parte de todo el mundo pero sobre todo en este caso

pues que efectivamente haya un compromiso humano un compromiso de medios materiales y económicos que posibiliten

con total y absoluta claridad y sin ningún tipo de problemas eta beste gauza bat lotu behar dugu horrekin qué es la administración de justicia pues la administración de justicia lo que tiene que hacer ese servicio prestar ese servicio prestarlo bien y prestarlo partiendo del interés y de los derechos de las víctimas no al revés partiendo de eso

no partiendo de las necesidades de los funcionarios no partiendo de las necesidades judiciales partiendo del interés de las víctimas porque es para satisfacer

para hacer que sus derechos se puedan llevar adelante para lo que está

euskal herria bildu lo que piensa es que la experiencia

nos aconseja hacer las cosas así tenemos que corregir lo que hay tenemos que conseguir que cuando las víctimas de violencia machista tengan que pasar porque no tienen otro remedio o porque así lo han decidido por el palacio de justicia

se sientan seguras se sientan protegidas entiendan sus derechos puedan ejercitarlos puedan plantear medidas y esta tarea es la que nos imponemos con esta propuesta esta es la tarea que euskal herria bildu

buenos días a todos en el pleno de control en el que se sustanció

que los socialistas tenemos en la lucha contra la violencia de género

muy atrás en el tiempo que mantenemos en la actualidad y en el que nos van a encontrar en el futuro hasta que no se logre la erradicación de cualquier tipo de violencia machista sobre las mujeres un compromiso que como no puede ser de otra manera está ligado de forma indisoluble a la promoción activa de las políticas de igualdad un compromiso activo de los socialistas y también

en el último pleno de control prevención detección atención protección y sensibilización social

en las políticas que se desarrollan en los departamentos del gobierno vasco

atraviesan todo el quehacer del gobierno el debate en términos estrictamente económicos es bajo nuestro punto de vista reduccionista y demagógico pero hoy se dirige la moción hacia la actuación concreta de la viceconsejería de justicia y podría decirle

me alegro que me haga usted esta pregunta porque nos ha resultado ciertamente gratificante llegar a una enmienda transaccional con todos los grupos de esta cámara para pedir a este departamento dirigió por una consejera socialista que sigue haciendo las cosas como las está haciendo y es que los socialistas no concebimos otra forma de desarrollar las políticas de justicia ni cualquier otra política

de principios tan fundamentales como es el principio de igualdad y no discriminación la viceconsejería de justicia y todo el departamento de trabajo y justicia y el conjunto del gobierno vasco aplican como no puede ser de otra manera el principio de igualdad y no discriminación así como la perspectiva de género

así que cómo no podemos estar de acuerdo cómo no vamos a estar de acuerdo en este punto de la enmienda porque lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo

públicas para comprobar su eficacia y su eficiencia para mantener aquello que funciona y para mejorar en lo que se detectan disfunciones o carencias y ello

como es este caso concreto porque está en nuestra concepción de la política y bajo este prisma

en este caso de justicia en la lucha contra la violencia machista y en cualquier otra política que tengamos que desarrollar lo hacemos lo saben y lo seguiremos haciendo por ello nos agrada coincidir con este planteamiento con el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario y como no puede ser de otra manera esto no lo concebimos sin la participación de las personas implicadas en los servicios que prestamos o en las medidas que ponemos en marcha

y un dato que puede corroborar lo que les comento es que la evaluación realizada este mismo año por ejemplo de los recursos judiciales en materia de violencia contra las mujeres han participado

o el instituto vasco de medicina legal el equipo psicosocial judicial el servicio de atención a la víctima

asociaciones de mujeres los colegios de abogados y procuradores víctimas de violencia de género que han acudido

y el propio ararteko no extrañará por tanto en esta cámara que compartamos el instar a que sigamos haciendo las cosas

ahora bien todo este compromiso de cómo hacer la política tiene que venir acompañado de las actuaciones necesarias para adaptar los servicios a las nuevas necesidades detectadas o corregir aspectos para una mejor atención y protección

en la enmienda transaccional el departamento de trabajo y justicia tiene en cuenta ya en este momento las recomendaciones que se realizan en la gestión de servicios y la implementación de las políticas y les digo esto porque como ustedes conocerán ya

de dos mil dieciséis con ciento ocho plazas para la administración de justicia toca ahora ultimar el acuerdo de la ope de dos mil diecisiete con un objetivo claro y es llegar a las cuatrocientos plazas en dos mil dieciocho en cuanto a la formación

en cursos específicos sobre violencia de género habiéndose formado en el curso concreto de violencia sobre mujer ciento quince funcionarios no debemos olvidar que se cuenta también

en los que de una forma teórica y práctica e impartidos por funcionarios experimentados en la materia

cuarenta y ocho funcionarios han sido formados bajo este procedimiento no solamente funcionarios sino también jueces y magistrados que están con

acceder también el año pasado y como todos ustedes saben y conocerán la próxima semana van a tener la oportunidad también de debatir en las jornadas que se van a realizar en homenaje a josé maría lidón en concreto los días nueve y diez sobre los retos que plantea en este momento el proceso penal

es decir si es posible una justicia orientada a la persona que con ponencias en las que van a hablar de la protección del menor y la prueba preconstituida las víctimas del delito y cómo evitar su revictimización

estos días en el debate que sobre estos asuntos hemos traído en este parlamento

durante este año para procurar y es verdad la necesaria privacidad a las víctimas o la no coincidencia con el victimario en espacios que garantice su seguridad

y es verdad las estructuras físicas tienen sus limitaciones por ello con ese objetivo también de poder garantizar

el servicio de atención a la víctima va a reforzar el programa de acompañamiento integral a las víctimas en especial a las de violencia de género de tal manera que la persona víctima que tiene que acudir al juzgado

para que se le dote a la persona de herramientas para afrontar el proceso con garantías con una información pormenorizada con una asistencia permanente con una comunicación fluida con una socialización de la espera

posibilidad de estar en la resolución de imprevistos acercándose de esta manera el servicio al concepto lo que es el acompañamiento terapéutico no me voy a olvidar tampoco porque ustedes lo conocen y se nombró también en la comparecencia

que lo calificó como la joya de la corona el servicio que presta el servicio vasco de gestión de penas con el programa gakoa para

y su implantación en las tres capitales vascas por tanto qué le estamos pidiendo

para atender las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas nuestra intención era que esta enmienda transaccional pudiera recoger esas medidas porque

de poner en marcha cuestiones nuevas pero no ha sido o no se ha aportado ninguna innovación con respecto a lo que ya está realizando el departamento y a lo que va a realizar el objetivo yo creo que lo compartimos todos mejorar y asegurar el acceso a la justicia de mujeres niñas

la no revictimización secundaria de las mismas el último punto que se ha incorporado ha dicho la proponente que viene a instancias del partido popular lo entiendo porque en el congreso de los diputados

ni eh bildu apoyaron el pacto para de estado contra la violencia de género un pacto que consideran cojo pero creo que lo han dicho ustedes aquí

previa a mí y es que cuando uno tiene que llegar a un acuerdo tiene que renunciar a

no se puede ir a la consecución de un acuerdo si no se tiene la altura de mira suficiente

que el pacto de estado contra la violencia de género significa un paso positivo y no lo dice solamente los grupos que le han dado apoyo en el congreso de los diputados lo dicen también esas asociaciones de mujeres esas asociaciones feministas que han podido participar en la realización de los trabajos que ha durado o que los han realizado a lo largo de todo un año es un pacto útil que tiene un compromiso económico

y me alegro de que lo hayan incorporado porque desde luego sí que es cierto que hay que instar a la colaboración del gobierno vasco con el resto de instituciones concernidas en este pacto para poner en marcha las medidas que allí han sido aprobadas desde luego sí sería bueno sí que es bueno o creo que eso es bueno y que yo también me congratulo en que este acuerdo vaya a salir por unanimidad que no tengamos capacidad de decisión verdad en otros ámbitos para haber dado un paso importante y también haber marcado la unanimidad que significa defender aquellas medidas necesarias
para luchar contra la violencia de género en cualquier caso es algo que nos compete a todos eskerrik asko

y todas compartimos que la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad y que es necesario continuar adoptando medidas para intentar y conseguir erradicarla y es cierto como mencionaba la señora arana que los datos corroboran

y ello no solo en los últimos meses sino que es un fenómeno que se viene dando en los últimos años y es debido a una mayor conciencia social fruto del esfuerzo de las propias mujeres y de sus organizaciones y también de las instituciones lo que hace que exista en nuestra sociedad una mayor visibilización y un rechazo colectivo de esta violencia en todas sus versiones

donde se establece entre otras cosas la creación de los juzgados especializados

que es de lo que hoy estamos hablando debiendo tener claro los ámbitos competenciales en materia judicial en el caso de nuestra comunidad autónoma con competencias de la materia la obligación es dotar a los juzgados y tribunales

además de esta responsabilidad del gobierno vasco de proveer medios materiales y personales a la administración de justicia también tenemos competencias que se atienden con servicios propios algunos se han mencionado aquí como el servicio de atención a la víctima el servicio de orientación jurídica y existencia jurídica gratuita

judicial el centro de coordinación de violencia de género el servicio vasco de gestión de penas con el programa gaukoa al que hacía referencia la señora castelo ahora mismo psicosociales o las unidades de valoración forense integral del instituto vasco de medicina legal todos ellos entendemos que desarrollan una importante labor con las víctimas de violencia contra las mujeres

y la ley vasca para la igualdad de dos mil cinco pionera ya que consta de un capítulo específico que regula la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y el sexto plan

todo ello interpretado de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos y el convenio de estambul del consejo de europa de dos mil once tal y como decía el señor ruiz de arbulo de la propuesta inicial de elkarrekin podemos pudiera inferirse que en euskadi partimos de cero en esta materia

y que está todo por hacer y que iba a ser precisamente a raíz de su iniciativa cuando el gobierno vasco se iba a tener que poner las pilas permítanme la expresión y empezar a trabajar decididamente en esta materia nada más lejos de la realidad como se recoge en la enmienda finalmente transada su propuesta entendemos que llegaba un poco tarde y a la vez con mucha prisa señora arana

el próximo lunes tenemos una visita a los juzgados de violencia de género de bilbao para ver la situación actual

para ver las distintas tipologías y tener un conocimiento directo de la situación real para ver si la situación real es

la caótica situación que usted plantea o tal y como le decía

es un problema importante pero no especialmente preocupante yo creo que entre una cosa y otra

en comisión la señora consejera de trabajo y justicia señora san josé para explicar

de esos dos departamentos y en concreto en lo referido al área de justicia entre otras cosas manifestó la necesidad de un proceso de auditoría y evaluación pública del sistema judicial en euskadi con criterios de parámetros basados y en su eficiencia eficacia y sostenibilidad y que garantice la tutela judicial efectiva además de afirma también que la atención a las víctimas de violencia contra las mujeres merece una especial atención

como son que se garantizará el apoyo material y económico a los juzgados

se reforzará la calidad de la formación fortaleciendo la sensibilización de todos los intervinientes en violencia de género garantizando

seguridad confortabilidad y privacidad en cumplimiento del convenio de estambul evitando el contacto entre víctima y victimario y a seguir reforzando los servicios de asistencia letrada especializada que evite retroceso y demoras en las declaraciones como decía

y sabe que aunque usted no estuvo en esa comisión sí estuvieron representantes de todos los grupos parlamentarios también del suyo elkarrekin podemos

que no dedicaron ni una sola palabra a este tema ni en el primer turno de intervención ni en el segundo

hace escasamente nueve meses sí a la problemática de los médicos forenses sí a la justicia gratuita sí a la especialización de la fiscalía para nuevos delitos y sí

en relación con las violencias machistas hace escasamente nueve meses y esto no nos hace pensar a los demás en la falta de compromiso de elkarrekin podemos en esta materia ni mucho menos

exigimos el mismo respeto y reconocimiento a la inversa en muchas ocasiones y por otro lado nos preguntamos si ha habido en este tiempo estos nueve escasos meses tantos cambios en la administración de justicia

como decían también con un tono excesivamente crítico desde nuestro punto de vista

además de tener que lamentar desde entonces varios asesinatos de mujeres en nuestra comunidad autónoma y graves episodios de violencia hacia las mujeres que no nos cansaremos de condenar y que deben de motivarnos

a finales del mes de enero se finalizó el informe ejecutivo de emakunde de evaluación de los recursos judiciales y asistencia letrada en materia de violencia contra las mujeres un informe que en cumplimiento del mandato del artículo cincuenta y uno punto dos de la ley vasca para la igualdad realiza una segunda evaluación

de la ya realizada en dos mil siete con los objetivos de conocer la realidad de las víctimas de la violencia en relación a su paso por el sistema judicial para identificar las mejoras necesarias teniendo en cuenta

como son menores diversidad funcional mayores inmigrantes etcétera y conocer y valorar la cobertura del marco legal según el grado de cumplimiento normativo y estratégico

es decir lo que usted y su grupo solicitaban hoy en el punto segundo

pero meses después de realizado la evaluación se ha realizado mediante el contraste con los diferentes operadores jurídicos

sesenta y seis personas entrevistadas y treinta encuestadas es decir lo que usted y su grupo demandaban en el punto cuarto de su propuesta de su moción

el citado informe hace un repaso exhaustivo de la actividad de todos los organismos relacionados con la materia y presenta una serie de conclusiones y recomendaciones

y la asistencia letrada en esta materia y asegurar la no victimización secundaria de esas mujeres lo que usted y su grupo solicitaban en el punto tercero de su propuesta

en el que decía que había que introducir el principio de igualdad y no discriminación así como la perspectiva de género

que ha quedado recogido y reconocido tal y como queda la enmienda final que la planificación de las políticas de igualdad

de los departamentos del gobierno vasco que cuentan con unidades administrativas de igualdad en todos los departamentos y además del citado informe otros hitos sobre la materia que es necesario mencionar el veintiuno de febrero el consejo de gobierno aprobó el programa de gobierno

una justicia de calidad el compromiso ciento cincuenta y siete hace referencia a mejorar la atención judicial a víctimas de violencia de género con tres iniciativas concretas a desarrollar y el veintiocho de febrero

de esta legislatura donde aparece un proyecto legislativo para la erradicación de la violencia contra las mujeres con el fin de reforzar y completar la prevención y la respuesta que estamos ofreciendo ante este tipo

por lo tanto y tal y como le decía anteriormente parece que su propuesta iba un poco tarde y con mucha prisa señora arana y finalmente ante la evidencia tozuda de los hechos se ha llegado a un acuerdo con usted y su grupo que luego ha sido ampliado a otros grupos parlamentarios de lo cual nos felicitamos con la inclusión también

acuerdo que como decía valoramos positivamente porque además de reconocer el trabajo realizado mira decididamente hacia la búsqueda de medidas y soluciones reales para seguir avanzando

no iba a intervenir pero a la vista de lo comentado

señora alexia hemos aceptado pulpo como animal de compañía con lo de seguir haciendo

una oportunidad no se equivoque ya que es evidente a la vista de los datos y de los casos y de los hechos y testimonios que no se está haciendo mucho por no decir

y espero que no sea nada como decía creemos que quieren hacer les damos la oportunidad de que hagan

tómenlo porque testimonios como los que ha comentado

jone existen y son muchos en mi interpelación a la consejera de trabajo y justicia le comenté una

y la voy a volver a decir aquí comparten la sala en la que tienen que esperar las denunciantes que es bastante pequeña en la que no se pueden abrir las ventanas y no hay ni agua ni comida

como no hay ningún espacio en el que puedan estar con su letrada para contarle lo que ha ocurrido recibir la asistencia jurídica y tomar decisiones

con las otras mujeres delante a veces muchas se echan a llorar y las otras que están pasando por lo mismo se contagian de las emociones y se vienen abajo

allí delante una situación dantesca esto lo cuenta una persona que trabaja en los juzgados si a usted le parece señora alexia y señor

ante esas situaciones debo de serlo

otra cosa así que señora alexia que el gobierno

me encanta que diga el señor del pnv perdone que no me acuerde de su apellido que las violencias machistas

le invito a que comente al gobierno esta apreciación para que lo tenga claro porque el otro día me decía que no es que si pensaba yo que era responsabilidad

erradicar las violencias machistas por supuesto porque las violencias machistas se sustentan en la desigualdad y es responsabilidad del gobierno erradicar la desigualdad

que pueden modificar los presupuestos en vez de seguir teniendo un cero coma dos en los presupuestos para temas de igualdad por favor

o a un cero coma uno por ciento que vendría muy bien

no nos hemos preocupado por el tema de las violencias machistas y los juzgados

en esta legislatura que no ha sido preocupación nuestra mire con el tema de los debates de los presupuestos

que digo textualmente nos gustaría preguntarles respecto al informe del impacto de género con los presupuestos donde se indica que los departamentos de nueva creación como es en este caso trabajo y justicia

administrativa de igualdad en su estructura para dar cumplimiento al decreto doscientos trece barra dos mil siete

a fecha de hoy todavía no hemos tenido respuesta nos preocupamos vamos poco a poco y seguiremos trabajando no se preocupe

una enmienda para crear presupuesto para hacer un estudio sobre el acceso a la justicia de niños niñas y adolescentes ustedes no la aprobaron

aquí podemos ver quién está o no trabajando o valorando o haciendo medidas para abordar esto está en su mano nosotros somos oposición seguiremos

en aquellas cosas que ustedes no están haciendo y señora alexia de verdad demuéstrenos que el gobierno con el que usted

puede y va a hacer cosas para mejorar los juzgados

gracias presidenta señorías solo dos apuntes boletín
oficial de las cortes generales boletín del senado número ciento treinta y uno del dos mil diecisiete

en julio de este año de estado contra la violencia de género que ustedes señora arana no quisieron suscribir según nos ha dicho hoy entre otras cuestiones

no tenía recogida ningún tipo de financiación contiene doscientos sesenta y cinco propuestas y medidas léase la doscientos sesenta y tres la financiación

de euros si eso es no tener financiación usted me contará yo entiendo que en este tipo de acuerdos tan generales a veces hay formaciones políticas que lo que quieren es tener una foto única y llevar un discurso ellos solos sin preocuparles el trasfondo

pero haga el favor de no criticar ese pacto y no decirnos

porque no tiene financiación y otras carencias que usted ha comentado que si se lo leyera despacio

en esa fotografía y señora goirizelaia

me sorprende que no le hayan llamado la atención por salirse del tema usted

y aprovecha el momento para solidarizarse con presuntos delincuentes pero en cambio pierde la oportunidad para solidarizarse y dar la enhorabuena a todos los agentes de la policía local de los distintos ayuntamientos del país vasco

que han hecho multitud de cursos de especialización y formación en violencia de género que hacen un seguimiento y un acompañamiento espectacular y de respuesta inmediata las veinticuatro horas del día a todas las personas que pasan por ese

acudir a las comisarías y a los juzgados es cierto por supuesto que hay carencias de infraestructuras en los juzgados y que son muy mejorables pero usted

de poner en valor de exaltar y de agradecer la labor de cientos de funcionarios especializados

juzgados de violencia o de aquellos juzgados que hacen las funciones de violencia en los palacios de justicia más pequeños que se desviven para ceder salas ceder espacios

que se llevan a las personas por los pasillos dedicados a los funcionarios y que no les dejan tirados en los pasillos señora

de presos y de delincuentes pero por favor haga justicia de verdad usted es una mujer inteligente y dé las gracias a las personas que suplen esas carencias que son lo que instamos con esta moción con este acuerdo hoy a que se mejoren dentro de los palacios de justicia porque existir existen muy mejorable es cierto pero desde luego todo el trabajo de los profesionales que se dedican a ello no lo podemos dejar de lado y no creo que

que se desviven en el cuidado y atención de las víctimas y si víctimas que no han tenido ese apoyo de esos agentes especiales y de los funcionarios del departamento de justicia que trabajan en los juzgados especializados y en los juzgados de instrucción comunes será porque esas víctimas no han sido bien asesoradas porque usted sabe que con una sola llamada de teléfono automáticamente tienen

las puertas y todo el elenco de posibilidades que el trabajo personal

ayuda a las víctimas en esos tragos tan duros que tienen que pasar muchas gracias eskerrik asko

ruiz de arbulo la verdad es que no tenía ninguna intención de intervenir en esta segunda parte pero ante sus interpelaciones

mire lo que hemos venido aquí es a explicar lo que no está bien lo que está mal y lo que creemos que se tiene que corregir

y eso es el planteamiento de euskal herria bildu

pues se trata de mejorarlas pero están bien ya con lo cual no tenemos que explicar lo que está bien sino lo que no funciona

desde la óptica de poner los mecanismos para que eso funcione

hay cuestiones que están en la mano de la consejería

pero es que en nuestro planteamiento global entendemos que tenemos que hablar de todo y entonces no tengo que felicitar a nadie porque mire usted

y se ha felicitado usted también por lo bien que hacen ustedes las cosas entonces pues ya está usted es muy autocomplaciente y lo hacen todo perfectamente bien

no es así es lo que está pasando y lo que va a pasar hoy que ustedes no hacen bien las cosas que ustedes quieren imponer sus tesis en todos los sitios también aquí

su enmienda venía además por esos términos como lo estamos haciendo todo superbién en madrid

con quien me parece que me tengo que solidarizar evidentemente con delincuentes como los que han sido juzgados estos días en madrid en la audiencia nacional con esos no me solidarizo yo

les apoyan ustedes le dan cobertura ustedes y además

responsabilidades con los corruptos con los que roban el dinero se solidariza el partido popular no euskal herria bildu euskal herria bildu se solidariza con los derechos

y con cataluña que es lo que entendemos que tenemos que hacer besterik ez

no íbamos a utilizar el segundo turno pero a veces cuando se llega a unanimidad es cuando

y me dice la señora arana o eukene que acepta pulpo como animal de compañía pues si acepta pulpo como animal de compañía porque la realidad es muy tozuda verdad y cuando se le pone la realidad delante

que girar hacía donde hay que reconocer las cosas porque se hace mucho se hacen cosas no es cierta esa visión tan sumamente desgarradora que nos muestra

hay un margen de mejora importante porque si no no estaríamos en este momento todo el mundo intentando ponernos en un acuerdo en el que seguir entonces a mí lo que me gustaría eran propuestas concretas y se lo dije cuando negociaba con usted la transaccional pero me faltan esas medidas concretas tanto en su propuesta original

porque más allá de que hagamos una evaluación más allá de que hagamos un plan de implementación de esas recomendaciones de la evaluación no hay nada más y usted me dice yo propongo voy a dar guerra con propuestas

cuando están los programas de atención y acompañamiento los programas de formación de concienciación de participación

surge de las medidas que se han ido poniendo desde hace muchos años y de esa concienciación social apuesta que se hace desde todas las instituciones para conseguir o para por lo menos intentar erradicar la violencia de género contra las mujeres entonces entre eso

de trabajo y justicia porque se nos dijo que había visitado todas las sedes judiciales se han puesto en marcha algunas adecuaciones pero también sabemos la limitación que

pero eso se podrá solventar también de otra manera por eso yo le avanzaba el concepto de lo qué es el acompañamiento terapéutico y ahí tenemos también el compromiso de muchos operadores jurídicos

salas separadas con biombos que tampoco es lo correcto se realiza con protocolos de acceso por itinerarios diferenciados y que haya un acompañamiento permanente de una persona de referencia que coja confianza con la persona y que le dé herramientas para superar

el acceso a la justicia o el transcurrir por la justicia en este o en otros casos siempre significa un tema traumático para quien tiene que acudir a ello más en este caso

yo reconozco que hacemos cosas y cómo no voy a decir que las hacemos y también reconozco que hay un margen de mejora yo lo que digo es que usted también debería de ser capaz de reconocer eso aquí congreso de los diputados porque tanto su grupo como eh bildu pero por diferentes motivos no han sido capaces de ver que doscientos sesenta y tres medidas algo de positivo tienen que tener algún paso hacia delante tiene que ser y no lo dicen las formaciones políticas lo dicen esas asociaciones feministas a las que ustedes tanto les gusta referirse

el avance total no claro que no pero lógicamente hay un montón de medidas y se las han comentado en modificaciones legislativas que son necesarias y que tienen que realizarse

a veces no tener tanto sarpullido por juntarse en un acuerdo con determinadas siglas y no tener que andar buscando siempre buscar la foto única

que otras cuestiones por eso le cuestionábamos el tema del pacto de estado pero yo en cualquier caso lo que me alegro es que elkarrekin podemos aquí quiera

que se tienen que poner en marcha las que nos competa como comunidad autónoma también se desarrolla aquí desde la colaboración

en ese sentido yo creo que lo que hoy teníamos que haber hecho aquí era solidarizarnos con lo que nos tocaba solidarizarnos que no es otra cosa que solidarizarnos con todas las víctimas de violencia de género

pero este punto tocaba lo que tocaba solidarizarnos con quién con quien sufre la lacra de la violencia machista

eskerrik asko legebiltzar buru andrea mire señora arana yo no he dicho

elkarrekin podemos por esta materia creo que si lo ha entendido así

una parte de ello que es que en la comparecencia del treinta y uno de enero en la que la consejera explicó las líneas generales de actuación para esta legislatura en materia de justicia elkarrekin podemos su grupo no dedicó ni una palabra a la situación que usted reclama hoy de la atención a las víctimas de género en la justicia quizás es que usted no estaba en esa comisión

este tipo de iniciativas creo también que especificado que esto y se lo voy a leer literalmente no nos hace pensar el que no dedicasen ni una sola palabra a este tema

esto no nos hace pensar a los demás en la falta de compromiso de elkarrekin podemos en esta materia ni mucho menos por tanto que le quede claro hablaba también de planteamientos que han hecho los cuales el partido nacionalista el grupo parlamentario euzko abertzaleak ha votado en contra

entonces yo creo que se le ha exigido aquí también el que sea más pragmáticos y que bajen a la tierra y que poco a poco

pretender conseguir todo probablemente nos lleva a no conseguir

finalmente no tenga dudas de que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que ocupa y preocupa mucho al gobierno vasco y a los grupos parlamentarios que lo sustentan que está en nuestra agenda política

como le hemos demostrado ya se están llevando a cabo por iniciativa propia y compromiso al gobierno somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer muchas cosas por mejorar hay que trabajar en la prevención y en el apoyo a las víctimas

buenos días gracias señora presidenta consejeros señorías presento esta moción consecuencia de la interpelación que le presentamos al señor consejero el seis de octubre y que se sustanció

contaminantes que se vienen produciendo al dominio público hidráulico de euskadi con graves consecuencias para la calidad de las masas de agua de la flora y la fauna acuática afectadas vertidos contaminantes incontrolados que se centran como nos decía el señor consejero en dos puntos principalmente la cuenca del zadorra en las zonas del zadorra salvatierra zadorra trespuentes

mendibil y durana en la zona de treviño zadorra la puebla también en inglares en peñacerrada alegria en matauco y en omecillo son puntos que no cumplen con los valores mínimos de calidad de agua exigidos por la directiva marco del agua también el primer tramo del nervión en el valle de ayala nos decía el señor consejero que es otro punto conflictivo y que también se puso de manifiesto en la interpelación dos puntos conflictivos que precisan con urgencia de infraestructuras de depuración pero que de momento están en proyecto la realidad es que esta no ejecución esta no acción en infraestructuras imprescindibles para el tratamiento

tienen consecuencias nefastas para la calidad de las aguas a estos ríos

que el porcentaje de masas de aguas superficiales del país vasco en buen estado ecológico ha mejorado en los últimos años sí la media ha mejorado

el estado ecológico según los diferentes indicadores últimos que tenemos

en controles anteriores está claro que una de las presiones más significativas que afectan a las masas de agua superficiales son las alteraciones por vertidos directos sin depurar o insuficientemente depurados tanto

y es una de las principales causas que en nuestra comunidad autónoma condiciona la consecución de los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica

prevenir el deterioro del estado de las masas de agua alcanzar el nivel óptimo de buen estado de las masas de agua y eliminar o reducir la contaminación por sustancias peligrosas y prioritarias esos son los objetivos de la planificación hidrológica que se ajustan a la directiva marco del agua en el caso

vertidos que se repiten sistemáticamente con datos y porcentajes de contaminación sobre sustancias químicas prioritarias que superan ampliamente el límite de contaminación y se repiten con indicadores negativos en los análisis que se hacen periódicamente

como he dicho antes son más negativos que los anteriores lo que puede tener efectos crónicos que así lo dice la confederación hidrográfica del ebro en sus documentos de análisis

como decía superando los límites de contaminación y detectados concreciones más elevadas que en años anteriores y los sedimentos con concentraciones muy elevadas por encima del límite de contaminación pero en mercurio en cadmio en cobre en cromo

esto es lo que da los resultados del análisis que hace la confederación hidrográfica del ebro si seguimos

hay que tener en cuenta que abastecen a vitoria a gasteiz en

de población y también a gran parte de la población de bizkaia

hectómetros cúbicos anuales y cantidad similar

hectómetros cúbicos anuales según los datos que yo he consultado al regadío es decir que un noventa y dos por ciento del total de la demanda de la cuenca

del zadorra se destina a consumo humano y al regadío de productos destinados

por lo tanto señorías creo que merece la pena que trabajemos profundamente en mejorar la calidad de estas aguas porque nos estamos jugando mucho el río más importante de euskadi por población a la que abastece que sufre vertidos contaminantes continuos que provoca que su efluente contamine el río por mal funcionamiento de la edar creo que merece la pena que contemos con

medidas para mejorar la calidad de esta agua que como décimos tiene unos niveles

contamos con una planificación hidrológica de cuencas tal y como la directiva marco del agua establece y esta planificación tiene como objetivo entre otros conseguir el buen estado de las masas

hidrológicos ya establece los programas de medidas sobre el estado de las masas de agua y además se marca unos hitos

dos mil veintiuno y dos mil veintisiete estos programas de medidas para mejorar el estado de las masas de agua tienen sus planes de seguimiento

del programa de medidas y para ello es imprescindible contar con puntos de control de la red de seguimiento del estado químico de los ríos vascos que

en euskadi son ciento cuarenta y cuatro de ellos treinta y seis se encuentran en álava y cuatro en el tramo del zadorra salvatierra ullibarri nuestra moción

objetivos que marca la directiva marco del agua que como hemos dicho era prevenir el deterioro de las masas de agua

la contaminación por sustancias peligrosas o contaminantes prioritarias por lo menos y como decía nuestra moción se centraba en profundizar en el control del estado químico y biológico del río zadorra aumentar los puntos de control

porque como ya hemos dicho y lo dice un estudio que ha hecho la upv que estos efluentes son principal causa de contaminación y hay que tener unos controles exhaustivos por lo tanto creo que nos estamos centrando en conseguir

y también en aquellos puntos como es el caso de la cuenca del zadorra tratar de eliminar la contaminación porque dice la confederación hidrográfica del ebro puede convertirse y eso sería mucho más complicado decir que los grupos de la cámara han hecho enmiendas a esta iniciativa que se ha llegado a una enmienda de transacción que también ha sido apoyada y consultada con el gobierno y que hay que decir que se ha mejorado sustancialmente

la iniciativa original porque se ha concretado en aquellos aspectos que ya se recogen en los planes hidrológicos pero que

demasiado amplios y con mucha literatura que no se llega

los puntos de acción y por lo tanto yo creo que estas enmiendas han mejorado mucho porque nos pone de manera muy clara y concisa aspectos y aquellos estudios y actuaciones que hay que concretar para conseguir el objetivo de mejorar la calidad de las masas de agua si me permiten voy a leer la enmienda de transacción porque me parece que es muy importante el acuerdo que se ha conseguido y muy

y la enmienda dice así el primer punto dice el parlamento vasco considera que la calidad de las aguas de los ríos es un buen indicador del estado ecológico de los cauces fluviales vascos por lo que insta al gobierno vasco y al resto de administraciones con competencia en la materia

técnicos económicos y administrativos que se están realizando en esta materia este punto es muy importante porque tenemos planes tenemos planes de seguimiento tenemos medidas

contaminados y hoy también hay que repetir hay que incrementar los esfuerzos técnicos los esfuerzos económicos y administrativos

también décimos en el punto dos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a presentar en el plazo de un año y en colaboración con el resto de instituciones con competencias en la materia

del país vasco entre otras cuestiones deberá contemplar un estudio detallado de las necesidades para la de la red de colectores

de euskadi las medidas necesarias para la puesta en marcha de un programa de

un programa de implantación del tratamiento terciario de aguas residuales

las inversiones necesarias para la implementación de al menos

de categoría uno y dos en los que se mida el caudal y los parámetros químicos y ecológicos

implementación de un programa de medida control y remediación de sustancias prioritarias y contaminantes emergentes las actuaciones a realizar para que los análisis del estado de nuestros ríos cuenten con un muestreo suficiente de biota y sedimentos

a tomar para realizar una completa valoración del estado ecológico de nuestras masas de agua superficiales incluyendo los análisis físico químicos los biológicos y los hidromorfológicos un estudio económico de las actuaciones

un calendario de ejecución de las medidas planteadas también esto es muy importante saber los plazos que cada medida se puede cumplir

el parlamento vasco insta al gobierno vasco vista la urgencia de la situación a incrementar con premura el número de puntos de control

implementando técnicas de control en continuo especialmente en los afluentes de la edar de agurain el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que

también se publique la información correspondiente a la calidad de los afluentes

incluyendo frecuencia y caudales mínimos en este modo

los expedientes abiertos el porcentaje de ellos que ha terminado en sanción el tipo de sanción

por vía penal y como último punto de la enmienda de transacción el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al resto de administraciones afectadas a trabajar de forma coordinada

el origen de los vertidos ilegales que sufren los cauces fluviales

sancionadores con diligencia y a establecer las responsabilidades administrativas y penales que correspondan en cada caso señorías

se ha conseguido esta enmienda de transacción con la colaboración de todos los grupos y la colaboración imprescindible del gobierno y del departamento de medio ambiente y está aquí el señor consejero pero tengo que citar a la señora viceconsejera porque yo creo que ha sido muy sensible

y decir que nos parece un acuerdo muy importante porque aglutina todas las medidas necesarias para conseguir los objetivos para tener unas masas de aguas de calidad buena muchas gracias

erantzuten digutena europar batasunean da de las cuatro zonas

con las aglomeraciones de alto nervión y busturialdea eta jarraitzen du dice toda vez que ninguna de las dos

ambas figuran junto a otras en un procedimiento de infracción más amplio que la comisión puso en marcha

en el paquete de procedimientos de sanción que llega el cuatro de octubre de la unión europea vuelve a advertir al estado que evidentemente tenemos siempre la tentación

pero aquí está claro que todas las administraciones tenemos responsabilidad porque ninguna de ellas ha cumplido del todo

esto tiene un resultado y el resultado es que independientemente que ura dentro de los medios que tiene esté haciendo lo que puede

hay que ponerlo de manifiesto y vemos también

se intenta explicar que se está haciendo un trabajo que evidentemente se está haciendo pero luego también cuando se dan los resultados los resultados se terminan maquillando un poco entonces se habla de

del estado físico de los ríos no es bueno tanto porcentaje del estado químico de los ríos no es bueno pero en realidad la directiva marco del agua lo que nos decía

de agua tenía que ser buena pero claro si vamos

de ríos que tenemos en la comunidad autónoma resulta que un estado bueno solo tienen noventa kilómetros porque entre que hay un

y el setenta y siete por ciento que no consigue estos parámetros uniendo todos los indicadores pues resulta que nos quedamos con que solamente un diez por ciento de nuestros ríos tienen un estado bueno cuando el cien por ciento tendría que tener ese estado para el año dos mil quince

egun on guztioi antes de entrar a referirme a la materia de la proposición de la moción presentada por el partido popular me gustaría hacer un breve comentario

quizás pedagógico sobre la importancia que tienen los ríos porque no cabe duda de que los ríos son la fuente y el sustento de la vida de un territorio

los seres humanos máxime en un territorio como euskadi donde los valles son tan angostos y exigen hacer una vida en torno a esos ríos en araba esta importancia de los ríos es todavía aun mayor y de hecho el río zadorra vertebra el territorio de este a oeste y de norte a sur

ha vivido durante décadas de espaldas a sus ríos en parte por desconocimiento de su importancia y en parte porque yo creo que hay una percepción de que vamos a tener agua dulce

de sobra indefinidamente y esto parece ser por desgracia que con el cambio climático no es tan cierto

hemos captado agua para regadíos sin respetar los caudales mínimos y lo que es más importante y es lo que nos trae hoy aquí hemos vertido todas nuestras aguas sucias tanto urbanas como de las actividades económicas a esos cauces de los ríos

a enderezarse se empezaron a construir las primeras depuradoras pero nos encontramos que ahora en pleno siglo veintiuno esta situación es de parón de parón en parte porque las inversiones para infraestructuras hidráulicas han caído a la mitad en los últimos años en principio debido a la crisis pero yo diría que también debido a la falta de impulso político porque al final es el impulso político el que hace que el dinero se destine a unas inversiones

el medio ambiente ha sufrido estas consecuencias de la crisis de los recortes presupuestarios y son las infraestructuras dedicadas al saneamiento de aguas

también ha influido por qué no decirlo la dispersión competencial que tenemos en este país tenemos las confederaciones hidrográficas dependientes del gobierno central tenemos a ura tenemos a las diputaciones tenemos a los ayuntamientos y en araba tenemos también a los concejos

pensando en que tienen dificultades presupuestarias y en quién se va a ahorrar el dinero provocan que uno por otro la casa sin barrer y nadie afronte esas inversiones

en qué se han materializado a día de hoy este retroceso en primer lugar en que tenemos colectores y depuradoras sin construir y aquí en araba el alto nervión y la zona de ayala es el paradigma de esta situación

y ahí tenemos la depuradora de salvatierra agurain que durante este verano nos ha demostrado que no solamente no funciona sino que además es incluso una de las causas principales de contaminación del río zadorra

nos hemos encontrado que recientemente que en el punto de vertido de la depuradora de

o hasta hace pocos años tenemos además cauces secos por captaciones desmedidas para el regadío y el río inglares

nos los ha demostrado periódicamente y tenemos además vertidos que ni se investigan

y a día de hoy en ura solamente hay una persona para la tramitación de los expedientes sancionadores qué consecuencias tiene todo esto bueno pues ya lo han dicho nuestros antecesores

de nuestros ríos y vertidos puntuales graves que acaban con la fauna que todavía sobrevive

es posiblemente el ejemplo paradigmático de esta situación aguas arriba de la capital tenemos que en el tramo entre agurain

la calidad es mala y debemos tener en cuenta de que ese tramo es el que abastece la reservas de agua para la mitad de la población vasca la mitad de la población vasca está sometida a un río que tiene una calidad mala aguas abajo de la capital tenemos el tramo entre crispijana y zambrana que aporta el agua de regadío de la mayor parte de las fincas agrícolas

de este territorio de araba un agua de regadío mala implica una menor calidad de las cosechas y es vox populi

y lo dicen las organizaciones ecologistas que algunos agricultores de álava se les están dejando de comprar las cosechas

en resumen tenemos que la mala calidad del agua no es un problema solamente para los peces sino que es un problema para la salud de las personas y para la economía del país y para la economía del país y esto es lo suficientemente importante como para que pongamos medidas qué soluciones hay bueno pues hay varias y son evidentes y yo creo que han quedado suficientemente reflejadas en la moción transaccional

los colectores y depuradoras que a día de hoy están sin construir por otro lado es necesario controlar que las depuradoras que ya tenemos funcionen y que funcionen bien

tendremos que mejorar en general el control de la calidad de las aguas tendremos que ser capaces de encontrar esas sustancias peligrosas que hasta ahora no se estaban midiendo y que

y tendremos por fin que investigar de una vez por todas los vertidos tendremos que buscar sus orígenes sus responsables tendremos que aplicar sanciones administrativas y penales

y todavía no se está haciendo nada en esa materia en conclusión nuestro grupo se felicita del acuerdo alcanzado felicitamos no solamente

en esta materia como en algunas otras con una buena predisposición y una actitud encomiable para que podamos alcanzar este acuerdo

no solamente a la viceconsejera y al consejero sino a todo el gobierno a que en los presupuestos de dos mil dieciocho sean capaces de percibir que las inversiones en medioambiente no son gasto son inversión son inversión en más y mejor agua potable

en más y mejor agua de regadío y por lo tanto en mejores cosechas y en resumen que tengan en cuenta que proteger el medio ambiente

y por otro lado en una mayor prosperidad social nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

gracias presidenta y buenos días a todos y a todas

que preocupa y que yo creo que ocupa a las instituciones vascas en las que el tema de las competencias yo creo que es el lugar en el que

lo que le corresponde hacer entendemos desde luego que ura es la que garantiza la calidad de las masas de agua los concejos en el caso de álava y los ayuntamientos son los responsables de las redes de abastecimiento y saneamiento de acuerdo a la ley siete barra mil novecientos ochenta y cinco de dos abril

y se configura como un servicio mínimo de obligada prestación y por otro lado tenemos a las diputaciones que tienen mucho que decir en este tema como todos reconocemos no tiene

ayuntamientos entendíamos que una vez leída y estudiada la iniciativa que planteaba la señora lópez de ocariz

esas propuestas de enmiendas a la totalidad que planteaban los grupos de la oposición nos parecía que la dificultad venía a la hora de ser capaces de separar cuales son las competencia que tiene cada una de las instituciones la enmienda que hemos conseguido firmar tres grupos parlamentarios creemos que solventa

el grupo eh bildu se plantean cuestiones concretas que el gobierno asume como compromisos a realizar a partir del planteamiento de esta iniciativa

para el tratamiento de aguas residuales y creíamos que a la hora de plantear las enmiendas incluso que a la hora de plantear la iniciativa que nos trae la señora lópez de ocariz quedaba un poco no se entendía realmente bien o

viera reflejada en este texto cuáles son sus competencias por tanto no me voy a extender mucho más puesto que compartimos el objeto de la iniciativa entendemos que la calidad

de las instituciones vascas puesto que cada vez más llegan a las instituciones las preocupaciones y las demandas

que al final son los que a veces nos llaman la atención sobre estos temas

y no se le acabe pidiendo siempre al gobierno vasco que asuma algo que realmente no puede hacer entendiendo que ura tiene un papel importante

una vez que se crea la agencia vasca del agua después de la aprobación de la ley de aguas del país vasco queda claro qué es lo que tiene que hacer y desde luego reconocemos la importancia que tiene el departamento de medio ambiente

todo lo demás reconocer que es un acuerdo importante parece que va a ser por unanimidad la votación de este tema reconocer también que

de todas las instituciones y que esta vez gracias a lo que aportaba eh bildu se van a aprobar propuestas concretas que el gobierno

de medio ambiente va a hacer y animar a los grupos parlamentarios a que en temas que nos preocupan a todos y en el que compartimos la preocupación de la filosofía general de la iniciativa original seamos capaces de hacer que la unanimidad nos lleven a ser eso una unanimidad y no buscar problemas donde solo hay acuerdos

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzar kideok egun on lo cierto es que hoy he tenido la tentación de traer

para mostrar la evolución de las aguas en los últimos años

el escenario un poco catastrófico que ha descrito

como no tengo gráfico voy a tratar de escribir la evolución general de la calidad de las aguas con dos datos que dio el mismo consejero en la interpelación que da origen

de los dos estudios que se hacen sobre dicha calidad que son el estudio de las condiciones químicas y del estado ecológico sobre las condiciones químicas casi el setenta por ciento

y en cuanto al estado ecológico en ochos años han pasado del treinta por ciento al cincuenta y dos por ciento los que están bien

de deterioro grave habrá quien le dé la vuelta

están en un estado no tan bueno y yo creo que nadie ha negado hoy el que existan margen de mejora en el cumplimiento de la dma verdad

sí que era un desastre hace muchos años debido a la contaminación

unas redes de depuración inexistentes y una artificialización de los cauces del río muy alta entre otras cosas por nuestra orografía

hay mucho monte se va a los cauces y a los entornos de los cauces de los ríos por tanto

factor es que hace cincuenta cuarenta años no existía conciencia ecológica

me voy a detener a analizar con cierto detenimiento los datos que todos tenemos a mano en la web de ura que es por cierto

y su nivel de trasparencia en los últimos años a través de varios premios verdad

podemos llegar a dos conclusiones la primera es que el estado biológico obtiene la peor calificación por los condicionantes que a los que he hecho mención antes y la segunda sería que la calidad química del agua mejora ostensiblemente a lo largo de los últimos años

y fruto también de un mayor control sobre los vertidos ilegales la señora lópez de ocariz ha traído el caso particular de álava al debate

pasan por álava por la depuradora de agurain y por la depuración del alto nervión esta necesidad

que en el apartado de calificación de potencial ecológico deficiente del estudio biológico

es del doce por ciento de bizkaia el ocho por ciento en gipuzkoa y el veinticinco por ciento en álava y esto también

a día de hoy son las dos principales prioridades que tiene el gobierno y que tiene nuestro país yo diría que por añadidura

quisiera también recalcar la gestión del ciclo del agua implica como se ha comentado anteriormente de todos los niveles competenciales de nuestro país

de instituciones no voy a repetir los actores empezando por los concejos y terminando por la unión europea y tampoco se me ocurre una realidad que refleje mejor

en el pasado yo diría que la única forma de redimirnos de la contaminación del pasado es ofrecer un marco de soluciones y en este sentido lo que se ha hecho hoy pues es un pequeño paso hacia adelante en ponernos de acuerdo y

las medidas que por otra parte ya estaban en la mente y en la mesa del gobierno

gurean azken hiru hilabetean datos más que preocupantes porque el trimestre pasado se ha destruido la mitad del empleo creado en el dos mil diecisiete

creemos que pueden ser datos que sean coyunturales pero estamos ante un mal escenario que empeora si tenemos en cuenta que el paro juvenil sigue despuntando que aumentan los hogares con todos sus miembros en paro y que disminuyen los que cuentan con todas sus personas ocupadas

preocupa la situación de las mujeres desempleadas

este es uno de estos temas del comer o del no poder comer que preocupan a nuestro grupo y mucho está claro que las cosas no están funcionando como debieran que no se acierta en las políticas de empleo y que desde luego ante la actual realidad socioeconómica

ya no vale pero además esta realidad es cruel

según los datos publicados por lanbide en julio alrededor de un setenta y uno por ciento de las personas desempleadas no reciben ningún tipo de prestación por desempleo

desde luego son datos escandalosos que reflejan claramente el fracaso de las políticas públicas del estado en esta materia una cifra y una situación que se deterioran y ya lo expliqué en la anterior vez a marchas forzadas

porque el número de perceptores de prestaciones se reduce mucho más que el de desempleados lo que provoca un aumento insoportable de las personas sin empleo y sin protección al mismo tiempo que baja la calidad de la prestación porque pierde peso las prestaciones contributivas

con una reducción significativa de la cuantía del gasto por persona beneficiaria porque se reduce también el importe de esas prestaciones contributivas

todo ello está provocando una caída acelerada del gasto por desempleo en los últimos meses que demuestra la dureza del recorte del sistema de protección de la reforma del dos mil doce y esto nos afecta notablemente estamos pues ante políticas exiguas y totalmente inadecuadas para impulsar oportunidades de acceso al empleo

de verdad vamos a permitir políticas que dejen de lado a miles y miles de personas se pueden hacer peor las cosas en esta materia desde luego parece difícil pero ya se sabe que españa nunca defrauda y todo es posible eta anabasa horren erdian milaka euskal langabetu milaka eta gu

eta eraginkorrak martxan jartzea a estas alturas y con estos datos y estas situaciones encima de la mesa qué justificación tiene mantener unas políticas de empleo que no resultan efectivas que no protegen a las personas que no responden a las necesidades de las personas desempleadas

las dejan sin protección es inaceptable estamos hablando del bienestar y de la dignidad de las personas betiko errezetek ez dute balio

nos viene de madrid porque señoras y señores no se pueden cumplir promesas con un estado raquítico no lo digo yo desafortunadamente lo decía pepe múgica pero es una gran verdad cómo va a abordar este gobierno sus compromisos

este reto cómo vamos a abordar el compromiso de protección que tenemos con estas personas si no tenemos plena capacidad para desarrollar políticas públicas

bai egun on bien nuestro grupo nuestra coalición nuestro grupo parlamentario

decidido firmar la transacción

a la moción que se nos presentaba básicamente porque estamos de acuerdo con los tres elementos que creemos que finalmente recoge pero es verdad también

introducir otra serie de elementos porque creemos que al hablar de una cuestión tan importante sobre las políticas pasivas de empleo y en concreto sobre la situación de la cobertura que las personas desempleadas tienen en este momentos nos parece importante nos parecía importante parlamento señalase también alguna serie de cuestiones en cualquier caso yo sí quisiera poner en valor el acuerdo y en tres

la transferencia de las políticas pasivas de empleo

que nosotros sí que queremos señalar que para nosotros el hecho de transferir las políticas pasivas de empleo no va a permitir por sí mismo el hecho de que nosotros seamos capaces de mejorar esa situación grave que la señora kortajarena ha descrito

sino que depende de cómo se haga no es tanto para nosotros el dónde sino el cómo pero efectivamente estamos de acuerdo en que se transfieran esas políticas

de empleo los otros dos elementos uno sería la crítica a la situación de la protección por desempleo de la situación de protección por desempleo y otras protecciones de nuestro sistema social que tienen las personas trabajadoras porque efectivamente compartimos el análisis de que la situación es mala

las personas desempleadas en este momento no tienen una cobertura suficiente y necesaria como deberían y un tercer elemento que era añadir también un poco en qué dirección pensamos nosotros piensa este parlamento porque pensábamos que era importante no solo quedarnos en decir

que la protección es mala sino decir al menos alguna serie de cosas

hay que mejorar las tasas de protección de desempleo y hay que mejorar las cuantías que finalmente reciben las personas desempleadas

en la transacción y por lo tanto nosotros la hemos firmado y lógicamente la votaremos a favor pero sí es verdad que pensábamos

en la que se encuentran las personas desempleadas en el conjunto del estado también aquí en euskadi estamos hablando de tasas de cobertura bajas muy bajas estamos hablando de cuantías medias de las prestaciones por desempleo y también de los subsidios por desempleo que son muy bajas la cuantía media ha ido bajando en el último periodo histórico

es una cifra que es de risa y que en el caso de euskadi además produce un elemento que es cuando menos curioso

que efectivamente en vez de dirigirse a cobrar la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo se dirija

y por lo tanto pues esto nos parece grave y criticable por eso nosotros pensábamos que

introducir sabíamos que este elemento que yo voy a describir ahora era el más complicado para introducir y por lo tanto lógicamente nos lo dejamos en la gatera pero para nosotros sí que es importante que cuando hablemos de estas cuestiones

hay uno que está en el centro y en el origen que es la cuestión ideológica

que el sistema de protección que tenemos sea fallido porque se estén haciendo mal las cosas nosotros pensamos que es fallido porque se están haciendo adrede las cosas así nosotros pensamos que la degradación del sistema de protección para el desempleo que tenemos en este momento responde a políticas concretas con objetivos concretos que vienen insufladas por determinados organismos de carácter

ideológico de marcado carácter ideológico neoliberal en este caso sí me voy a referir a esto

a la banca y a la patronal que normalmente nos suelen decir

que se hagan y por lo tanto nosotros pensamos que la situación grave de la cobertura por desempleo y la situación grave

responde a unos objetivos concretos y a una intencionalidad concreta no se trata solamente de errores se trata de que esas políticas son las que se quieren implementar y así lo han demostrado diferentes gobiernos en el conjunto del estado de manera especial los gobiernos del partido popular y nosotros pensamos esto porque pensamos que con la protección por desempleo el hecho de degradarla

concreto y es el objetivo de que ante una mala cobertura por desempleo las trabajadoras y los trabajadores tengamos que aceptar empleos permítanme la expresión es decir empleos precarios porque cuando estás en la tesitura de una mala prestación por desempleo o un empleo precario finalmente elegimos por el empleo precario y este es el objetivo de un sistema que algunos conciben efectivamente como asistencial y que no lo es y que no debiera serlo

se hagan donde se hagan tienen que ser diferentes y tienen que ser contrarias tiene que haber una buena cobertura para las desempleadas y los desempleados no desde un punto de vista asistencial

obligue al mercado a cambiar también de políticas

nos permite no aceptar cualquier tipo de trabajo o el primer trabajo que nos ofrezcan aunque no sea el adecuado y por lo tanto esto tendría una consecuencia directa que

mejores puestos de trabajo mejores condiciones laborales porque serían ellos los interesados en que vayamos a los puestos de trabajo por lo tanto nosotros se hagan donde se hagan estas políticas pasivas de empleo ya digo

lo que nos parece importante es cómo se hagan y cuáles sean sus objetivos y en nuestra opinión deberían ser contrarios a lo que ahora se está realizando

las causas materiales concretas que nos han llevado a esta situación que describimos ustedes ya las conocen

la reforma laboral que ha pauperizado el mercado de trabajo las condiciones laborales y por ende las cotizaciones que finalmente hacemos y los recortes directos en las propias prestaciones el más destacable el último la bajada del

de diez puntos que es brutal para un trabajador que pasa a cobrar la mitad de la base de cotización de lo que trabajaba si se trata de manera especial en una familia donde ese es el único ingreso que hay es una bajada muy

lo que sí queríamos señalar también finalmente es que no quisiéramos que se confundiera nuestra crítica a la situación del sistema y a la intencionalidad que como he dicho hay

al sistema en sí mismo para nosotros un sistema de protección de solidaridad interterritorial es bueno para nosotros es bueno que haya una hucha a la que los trabajadores y las empresas gracias al trabajo que hacemos las y los trabajadores puedan cotizar y engordar

para proteger las situaciones de desempleo de las y los trabajadores nuestra crítica es a cómo se está llevando a cabo este sistema de protección

este sistema de protección y eso queríamos dejarlo claro porque a nosotros también nos parece que tener sistemas de protección de este tipo es muy importante

y hay que hacerlo con objetivos concretos que en nuestra opinión es que las trabajadoras y los trabajadores tengan una muy buena cobertura por desempleo

para que no se vean como decía en esa tesitura de aceptar cualquier tipo de trabajo y por lo tanto

mercado de trabajo siga siendo precario planteábamos también en la enmienda original algunas cuestiones

sobre todo en el sentido de no tapar agujeros respecto a lo que creemos que tiene que hacer el sistema de protección social sino respecto a corregir

en cuanto a la carestía de la vida en este sentido nos parece interesante que también se puedan buscar esas fórmulas y nos parece interesante y finalmente de alguna manera se ha incluido al pedir

se posicionase se posicione claramente sobre lo que hay que hacer respecto a esta cuestión más allá de solo transferirlas nos parece importante porque la realidad es concreta como diría lenin y la realidad concreta de las desempleadas y los desempleados en este momento y mientras resolvemos la cuestión de la transferencia

es muy mala y por lo tanto creemos que es bueno que este parlamento lance mensajes también de que hay que cambiar esas políticas y de que hay que corregirlas

sí gracias presidenta mi grupo parlamentario en que el sistema de protección por desempleo existente es insuficiente y limitado e incrementa la vulnerabilidad de los afectados

desde el dos mil doce y esta situación está castigando fundamentalmente a las mujeres a los jóvenes y a los mayores de cuarenta y cinco años por ser los colectivos más castigados hoy con empleos de corta duración con contratos

que impiden en muchas ocasiones que se cotice lo suficiente para poder acceder incluso hasta cobrar la prestación por eso nuestra posición

reivindicar también el instrumento que permite reforzar las políticas de inclusión social y los socialistas creemos que el mejor camino es el desarrollo del estatuto contamos desde hace dos legislaturas bajo el mandato de patxi lópez con las políticas activas y contar con las pasivas en los términos previstos en la ley que es el estatuto nos permitiría mejorar esas herramientas inclusivas eso es

hoy en un análisis realizado por lanbide conocemos que del total de las personas desempleadas el veintiocho coma nueve por ciento de ellas están percibiendo alguna prestación

de los mismos no recibe prestación alguna del estado y además el porcentaje de personas

sin ninguna cobertura supone el veinticuatro coma ochenta y uno de las personas paradas pero esta iniciativa se centra solo en el nivel de cobertura de la prestación y subsidio por las personas desempleadas y eso a nuestro juicio es sesgar un poco la situación prestación y subsidio además

en la actualidad del estado español pero que deben ser mejoradas desde luego estamos de acuerdo sin ninguna duda porque

hasta esta fecha las han ido empeorando y es sesgada porque eso

desprotegidas dentro de nuestro sistema ya que el sistema vasco de protección interviene para paliar esta situación pues consigue llegar a esa población que está en mayor situación de riesgo un noventa y seis coma seis por ciento del gasto de la renta de garantía de ingresos la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social llega a este colectivo es por esa razón

que puedan paliar esa situación y nosotros contamos en euskadi con un sistema de garantía de ingresos de los mejores del estado español ha permitido paliar y reducir el aumento de la pobreza generado en los últimos años como consecuencia de la crisis de una reforma laboral que ha permitido reducir los salarios y por el aumento de la temporalidad y la parcialidad en los contratos entre otras razones sin esa herramienta el nivel de pobreza desde luego sería mucho mayor y además facilita la cohesión social

sistema se diseñó para paliar las insuficiencias del mercado de trabajo y vivienda precisamente y está cumpliendo

queremos modificar nuestro sistema para mejorarlo estamos ahora en ello ahora bien el sistema vasco de protección se centra en un doble derecho por un lado

y por otro la inclusión social mediante políticas activas de empleo ha de seguir siendo así con el fin de conseguir que las personas no se cronifiquen en esa situación y puedan acceder al mercado laboral lo antes posible por tanto

sino que cuenta también con la prestación de garantía de ingresos para aquellas personas que cumplen los requisitos exigidos para la misma y

para atender necesidades de familias vascas y las ayudas de emergencia social es por ello por lo que el nivel de cobertura social para quienes buscan empleo es en euskadi

seguir mejorando porque todavía hay muchas personas que viven situaciones muy complejas y difíciles el gobierno reclama en el informe

del régimen económico de la prestación por desempleo y esta gestión del sistema de protección económica

incluye la totalidad de las prestaciones especificas por desempleo tanto a nivel contributivo como

en euskadi ya se desempeña desde el año dos mil doce aunque se materializó por el real decreto de cinco de noviembre del dos mil diez las funciones de intermediación laboral y de gestión de las políticas activas de empleo por lo que el traspaso de la gestión del sistema de protección

lo que llamamos políticas pasivas mejoraría con todo la seguridad la coordinación entre las funciones desempeñadas actualmente tanto

por la estatal y permitiría una política de empleo y una atención al servicio público de empleo con mayor dosis de congruencia y se suma

que como he dicho son una herramienta imprescindible para incrementar

de personas con más dificultades para poder acceder al mismo es por ello por lo que en la enmienda transaccional que hoy hemos firmado solicitamos al gobierno la transferencia al gobierno del estado las transferencias de las políticas pasivas de empleo y

al resto de grupos parlamentarios al grupo eh bildu

al grupo nacionalista vasco que entre los cuatro hayamos conseguido poder firmar hoy esta enmienda transaccional habiendo hecho un importante esfuerzo por parte de los diferentes grupos para llegar a acordar

el texto definitivo nosotros al principio pedíamos algo más en nuestra enmienda a la totalidad la enmienda que presentamos el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista

ya que está recogido dentro del acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista proponíamos asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social porque considerábamos importante

aquí ya presentamos en el pleno del dieciséis de marzo ante otra iniciativa una proposición no de ley del grupo eh bildu relativa

el gobierno para completar y dignificar las pensiones más bajas esta petición en aquel pleno

esta enmienda ni ninguna otra en aquel pleno por eso creíamos oportuno pues haberla podido meter aquí pero en aras a buscar desde luego el consenso

de lo que planteamos en un primer momento y nosotros considerábamos que lo más importante desde luego era

que lo hemos conseguido y por tanto todas estas medidas que en su conjunto se recogen dentro de esta enmienda

el grupo eh bildu y elkarrekin podemos en su conjunto pueden ser beneficiosas en las políticas de empleo nuestra comunidad autónoma y por tanto
yo creo que es un buen acuerdo nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

compartiendo que la cobertura del estado para las personas desempleadas es muy escasa creo que es de justicia reconocer que la situación de este colectivo en euskadi es menos mala o mejor debido precisamente a que la ley protege a estas personas completando y otorgando ayudas cuando se agotan las estatales porque en euskadi tenemos claro

debemos hacer un esfuerzo y obtener unos mínimos que permitan a todas las personas

ha defendido y ha trabajado para obtener las competencias pendientes de transferir

porque estamos absolutamente convencidos que cuando las mismas son gestionadas desde euskadi se ejercitan infinitamente mejor transferentzia arloan

gobernu programan hau da gure oinarrizko zuzenketaren hirugarren puntuaren edukia y no cejaremos en el empeño hasta conseguirla pero como ha explicado la señora sánchez en aras de un consenso mayor la hemos

el sistema estatal de protección por desempleo como se ha explicado tiene como eje central la prestación contributiva con la que pretende compensar las pérdidas del salario en las situaciones de paro

el estado contempla subsidios destinados a las personas desempleadas que no reciben prestación por desempleo para poder dar una respuesta más coordinada y congruente a fin de dar una cobertura más eficaz a las personas desempleadas en euskadi solicitamos la transferencia de la competencia de las políticas pasivas de empleo

es limitado e insuficiente y que incrementan la vulnerabilidad en euskadi

contamos con una herramienta pública como la renta de garantía de ingresos que compensa ese déficit por lo menos en parte

por la crisis económica y por la mala cobertura de las personas desempleadas el sistema de protección vasco es el principal colchón social de las familias hoy en riesgo de pobreza de euskadi con ello se visualiza el papel central de estas prestaciones para canalizar y objetivar un modelo social cohesionado como bien saben ustedes el sistema vasco de protección está basado en el doble derecho por un lado la ayuda económica

mediante políticas activas de empleo el sistema de protección

tanto para paliar las insuficiencias del mercado de trabajo y de la vivienda así como las insuficiencias del sistema

pensiones y desempleo para eso fue creada la renta de garantía de ingresos para proteger a este colectivo y para cubrir las carencias que el estado no ponía o no protegía

gracias señora presidenta buenas buenos días buenas tardes y a todos decía

para el partido nacionalista vasco que sostiene al gobierno vasco claro porque aquí todo es exigir al gobierno de madrid y reclamar las competencias

señor hernández de verdad si uno lee las iniciativas originales y sobre todo

la verdad es que uno cuando llega aquí muchas veces ya no sabe si está en el parlamento vasco o está en el congreso de los diputados porque se exige al gobierno de madrid

al gobierno vasco yo creo que estaremos de acuerdo todos en que una política de empleo su objetivo

esta es la gráfica de lo que ha hecho el gobierno del partido popular

del número de ocupados esto es hacer política de empleo hoy conocíamos verdad

más en los últimos doce meses en españa y que la tasa de paro ha bajado casi un punto y que ha descendido en ciento ochenta y dos mil seiscientos personas sin embargo en euskadi ha subido en

puntos más que el índice anterior

supongo que la responsabilidad en positivo de que suba la población activa no es del gobierno del partido popular pero de que el paro suba en euskadi seguro que también en cambio la responsabilidad es del partido popular y con respecto a records bueno

es verdad como decía y como muestra la gráfica que estamos viviendo tiempos de recuperación económica aunque es verdad que queda mucho por hacer

aquí que la protección por desempleo en españa

en primer lugar hay que decir que es una competencia de la administración general del estado al ser parte del sistema de seguridad social y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto diecisiete

preservación de la unidad y solidaridad del sistema y que ello viene simbolizado en el principio de la caja única y qué coberturas se dan aunque la señora arregui lo ha

efectivamente que en función de las cotizaciones que se han acumulado pues se puede solicitar esta prestación por desempleo en caso de que las prestaciones o las cotizaciones no hubieran sido suficientes se podrán acoger al subsidio por desempleo al que también tendrán lugar aquellos que hayan terminado la prestación contributiva y además

podemos decir que existe el subsidio por insuficiencia de cotización la ayuda familiar el subsidio para emigrantes retornados el subsidio por mejoría de una invalidez

en prisión y por último están las ayudas extraordinarias para desempleados que son aquellas que se pueden acoger cuando se haya agotado

paro entre las que están la renta activa de inserción el plan prepara y el programa extraordinario de activación para el empleo con relación a este último plan

el veintisiete de julio se conoció la sentencia del tribunal constitucional en relación con un recurso que interpuso el gobierno vasco y ahora pasa a ser

en este primer ejercicio era difícil para las comunidades autónomas hacer frente a las mismas se ha dado una encomienda de gestión

hasta el treinta de marzo se encargará de esta gestión

por lo tanto esa prestación insuficiente y limitada que probablemente

adoptar medidas contra el déficit no siempre queridas no siempre desde luego populares pero que eran necesario para sacar a delante el país

las personas desempleadas no siguen sin cobertura aquí se dice que si tuviéramos las competencias

lo haríamos mejor claro lo que se calla el partido nacionalista vasco es como se calla en otras competencias que son estatales que las demandan pero que no dicen si las hicieran

cómo las harían qué importe tendrían las prestaciones contributivas qué importe tendrían

eso no lo dice o desde luego si lo dicen luego habría que ver si lo aplican porque

una de las competencias más demandadas y que iba a ser la panacea y que iba a suponer que euskadi se iba a colocar

que en este momento son desarrolladas por lanbide y de verdad tener nosotros la competencia

que no que parecía que iba a ser inmediata y el gobierno vasco se pone un objetivo de tasa de intermediación laboral que no lo cumple que no lo cumple por eso le digo que probablemente usted baje aquí y diga que las prestaciones por desempleo serían pero luego habrá que ver si eso

por qué lanbide está cumpliendo las expectativas que en su momento despertó pues

no es un instrumento útil para la búsqueda de empleo el propio consejo económico y social vasco en su dictamen sobre el plan estratégico de empleo señalaba

mejorar el sistema y decía que la gestión de los programas es muy dificultosa que la renta de garantía de ingresos satura el organismo que los programas

estratégicos van cambiando que falta la evaluación de los programas que falta una evaluación de los servicios vinculados a dichos programas que faltan servicios dirigidos a las empresas

ver cuáles son sus necesidades porque ello es imprescindible y a pesar de que los distintos planes de empleo recogen esto eso luego es pues no se cumple y esto no lo digo yo está como digo en el dictamen

y señala también que el plan estratégico no lo recoge pero que es fundamental para mejorar la intermediación y la captación de ofertas de trabajo como decía lanbide no es un instrumento útil para la búsqueda de empleo los ciudadanos no confían en lanbide para encontrar empleo no creen que les pueda ser útil

ni los ciudadanos es que ni el propio gobierno confiaba todos recordamos verdad las palabras del viceconsejero que señalaba que desde luego a sus hijos no

nunca nunca y la verdad es que como les decía pues tienen toda la razón en no confiar en lanbide porque solo tres de cada diez vascos

por lo tanto al fracaso que supone lanbide en la gestión de la renta de garantía de ingresos con noticias hay que sumar el fracaso como instrumento adecuado para la búsqueda de empleo por lo tanto eso de que si la competencia se ejerciera aquí

que lo ponga muy en duda ahora sí que les tengo que reconocer una competencia

que el resto de la oposición solo mire a madrid y a ustedes ni media critica y les liberen de una responsabilidad que este grupo sí considera que tienen que es conseguir que la búsqueda de empleo de los vascos sea

para nosotras sí es importante dónde se deciden las cosas claro tenemos concepciones diferentes en ese sentido pero compartimos su preocupación sobre el cómo comentábamos que entendíamos que tenemos que replantearnos las políticas de empleo y de protección ambas y ahora consideramos y lo dije en la interpelación que tenemos un momento una oportunidad muy importante en ese sentido porque tenemos abiertas unas discusiones

viene la discusión de lanbide vienen los planes y las estrategias de empleo y bueno nosotras creemos que podría ser el momento para pensar

coherentes que busquen esos equilibrios entre la promoción y la protección pero siempre desde un punto de vista de los derechos que yo creo que eso es un elemento en el que usted también está de acuerdo y nosotros también compartimos y nosotras que no se trata de errores que son políticas intencionadas eso también lo compartimos nosotros y desde luego que son modelos políticos que nosotras no podemos compartir

todas nos hemos dejado muchas cosas por delante en este acuerdo para llegar a acuerdos y que es muy importante porque hemos llegado a este acuerdo desde puntos de vista muy diferentes para nosotros el estatuto

está más que agotado liquidado y diría

nos pone un poquito en esa dirección y compartiendo esa idea de situaciones concretas con la que terminaba el señor hernández

nosotras esperamos transitar hacia un nuevo estatus en el que tengamos competencia plena en materia de empleo y protección y

a nadie eso es lo que nosotras esperamos y el sistema y esto lo dijo también la consejera sí se diseñó para corregir las deficiencias que otros sistemas puedan tener pero yo no tengo claro y no puedo compartir que esté diseñado para cubrir los agujeros

las heridas que generan políticas nefastas como las de madrid

nosotros sí vamos a exigir al partido nacionalista vasco y a su socio el partido socialista que vengan aquí a hablar de políticas activas a hablar de lanbide que podamos hablar sobre las estrategias de empleo y les exigiremos al máximo como lo hemos hecho siempre

en los próximos meses y les criticaremos porque ya he dicho también

que esas políticas activas tampoco están funcionando aquí y que también las políticas activas las tenemos que repensar lo he empezado diciendo y mencionando a lanbide y de todas formas por ejemplo en esa estrategia de empleo ustedes firmaron con el partido socialista y el pnv un acuerdo que resultó bastante barato con lo cual

y desde luego venir aquí a sacar pecho de sus políticas de empleo yo ya le he dicho lo que nos parecen las políticas de empleo de madrid las políticas neoliberales que está liderando su proyecto

nueva república vasca que creemos que está a punto de llegar eskerrik asko eskerrik asko

zurea da hitza sí me gustaría señalar solo tres cosas porque creo que

hombre nosotros sí que hacemos críticas al gobierno en materia social y en materia de protección social

a este parlamento era el debate de un asunto de las competencias en este momento

en el gobierno del conjunto de españa y por lo tanto pues lógicamente nos teníamos que referir fundamentalmente

a los que les moleste que hablemos de cosas de españa como parte de ese estado del que somos en esta comunidad autónoma y por eso nosotros hemos centrado nuestro discurso en criticar el modelo que tenemos

solución mágica en sí misma la transferencia de las competencias nosotros estamos de acuerdo creemos que es bueno transferirla pero desde luego que a nadie le vamos a vender crecepelos diciendo

que la situación de las desempleadas y desempleados de euskadi sea mejor por el simple hecho de traerlas nosotros pensamos que no pero lo que sí que teníamos que indicar claramente es que las políticas que se están desarrollando y sobre todo las que han desarrollado ustedes el partido popular

pensamos que no son efectivamente errores todo el mundo se equivoca pero no es cuestión de errores ustedes tienen una política concreta que yo antes he descrito con unos objetivos concretos y nosotros nos gustaría desarrollar las políticas

de las desempleadas y mire usted señora llanos

la que más me chirría o la que más me cabrea es una que ha dicho usted que es la de que usted de alguna manera ha admitido que se han hecho recortes en esta cuestión y ha dicho que es que había que corregirlo

pero es que ustedes siempre corrigen ese tipo de cosas a costa de los mismos de los trabajadores y de los de abajo y ustedes pues le han metido la tijera a una cuestión que es necesaria para muchísima gente que lo necesita de verdad y mientras tanto mientras estamos mirando

mientras tanto la opinión pública no se está enterando de cómo en un juicio se está demostrando que ustedes han robado a manos llenas por lo tanto no hay dinero para algunas cosas

hay dinero para llevárnoslo a nuestros bolsillos que es lo que hacen ustedes y por lo tanto

el de la falta de recursos económicos para desarrollar políticas económicas de protección a los desempleados mejores no es una cuestión de dinero es una cuestión de a dónde queremos que vaya el dinero que recaudamos el dinero del conjunto de las y los trabajadores del conjunto del estado

bueno señora llanos estoy con el señor hernández que evidentemente la transferencia de las políticas pasivas de empleo a quién se las vamos a pedir pues se las vamos a pedir al gobierno de españa que es el que tiene que hacer la transferencia

no se puede mirar para otro lado si estamos pidiendo una transferencia pendiente hay que mirar y pedírselo al que tiene la facultad y la potestad

de acuerdo con nuestra comunidad autónoma ustedes han hecho reformas que han empeorado desde el dos mil doce hasta aquí toda la situación del sistema de protección por desempleo

no no no se puede transferir

alterar el vigente sistema de gestión liquidataria y recaudatoria de la cotización

juntamente con las cuotas de la seguridad social por la tesorería general de la seguridad social a las que se refiere el artículo veintiuno del texto refundido de la ley general de la seguridad social pero no estamos

estamos demandando la transferencia a las políticas pasivas de empleo que es otra cuestión diferente por otro lado usted ha hecho referencia

de acuerdo con el señor hernández a que se vieron obligados a hacer esas reformas desde el dos mil doce y seguir haciéndolas hasta ahora porque venían de un déficit vamos a ver

ustedes han ido adoptando una serie de medidas dentro de la reforma desde la reforma del dos mil doce hasta aquí que han supuesto también reducción de los ingresos como son medidas que permiten reducciones de salarios como nunca producido antes en españa esas reducciones de salarios suponen reducciones de cotizaciones y por tanto reducciones en la recaudación se consiguen en los ingresos y además han fomentado para conseguir así reducir

la utilización de contratos a tiempo parcial modificando y remodificando también para dar todas las posibilidades del mundo para que los empresarios puedan efectuar esos

conseguir menos ingresos entonces ustedes también son responsables de que existan esos menos ingresos porque han adoptado una serie de políticas que han conseguido recaudar menos en las cotizaciones a la seguridad social

esa decisión pero no le echen la culpa siempre a otros de las decisiones que toman porque ustedes son responsables de las medidas y de las reformas que han realizado por ustedes mismos durante estos últimos años y sin más yo creo que centrando el tema

en la proposición de hoy en la moción presentada hoy yo creo que la enmienda transaccional que hemos conseguido con el esfuerzo de todos los grupos la transferencia de las políticas pasivas es buena que supone un avance y que puede mejorar las políticas que se pueden realizar desde nuestra comunidad autónoma y por tanto pues estoy contenta

señor hernández usted reclamaba las políticas pasivas de empleo para que se hagan mejor para que se hagan de otra forma y nosotros estamos de acuerdo en eso que

sí es importante y quiénes ejerciten eso podemos discrepar y evidentemente que el que se transfiera esa no es la varita mágica no es la panacea para que se haga mejor pero desde luego la experiencia nos dice que las transferencias que hemos

y que venimos ejercitando se hacen bastante infinitamente mejor que del estado respecto al partido popular señora llanos decirle que si usted quería instar al gobierno vasco a hacer lo que quisiera podía haber presentado una enmienda cosa que no ha hecho así que es muy fácil luego criticar al resto de grupos diciendo que

y en cambio a nosotros nos lo achaca como una virtud lo cual no era difícil porque como bien han dicho los demás a quien hay que instar la transferencia

que en este caso es el gobierno del estado por lo tanto gracias por el cumplido pero no era difícil en este caso en cuanto a los datos usted

creo para ser justos debiera de ser y lo decía la señora rica el otro día en una comparecencia que tuvimos en la comisión de empleo hay que

pero lo que usted ha omitido hoy no ha dicho es no se ha referido para nada a la tasa de paro porque

en euskadi es del once coma cincuenta y seis por ciento cinco puntos por debajo que la tasa de paro del estado que alcanza el dieciséis coma treinta y ocho por ciento

comunidad autónoma con la tasa de paro más baja del estado por detrás de baleares aragón y nafarroa donde curiosamente en ninguna gobierna el partido popular

y el debate de hoy no se refería a lanbide aunque ustedes últimamente

es la matraca con la que nos vienen todos los días pase lo que pase lanbide lanbide todo está fatal todo mal en lanbide pues lanbide

que es mejorable y en eso estamos y llevamos toda la legislatura trabajando en ello tanto desde el parlamento como desde el gobierno y la tasa de intermediación

en una evolución desde que se creó lanbide hasta hoy la tasa de intermediación ha subido mucho y está a niveles de los servicios públicos de empleo del resto

y también a niveles muy cercanos al resto de servicios públicos de empleo europeos y casi

de las personas que acuden a lanbide a formarse o a informarse consiguen un empleo que todavía no es de la calidad que nos gustaría pues también es así pero lo consiguen la intermediación puede ser directa o a través

que acuden a lanbide y no se preocupe porque si usted trabaje para que se nos sea transferida

la transferencia de las políticas pasivas de empleo y ya verá cómo la ejercemos bien y entonces hablaremos de cómo cuánto etcétera no vamos a ir adelantando acontecimientos primero la transferencia y después ya veremos

del partido nacionalista vasco es de sobra conocido los que pasa es que en este

luego ya veremos porque probablemente esa panacea de la transferencia no sería tal por qué ha hablado de lanbide porque se lo decía porque ustedes hablan siempre de

funciona mucho mejor pues oiga no políticas activas de empleo no tres de cada diez

hombre ya me dice que es que se puede hacer de forma directa indirecta hombre y porque pasaba por allí no pasa por la puerta de lanbide encuentra empleo

diez metros más y me va a decir también que es lanbide la que ha conseguido intermediar en la concesión de un empleo que no lo décimos nosotros que lo dicen

y no se encuentran con instrumentos que no se encuentran con instrumentos para encontrar empleados que los cursos de formación no son los adecuados y bueno eso de que todas las competencias pues también hemos tenido el informe pisa en educación verdad hombre pues no sé yo si también es para sacar pecho de ese

y decía que cómo podíamos venir aquí a sacar pecho pues mire sí ya se lo digo esto

el gobierno del partido popular las arcas públicas y la destrucción de empleo cuando llego al gobierno porque usted decía señor hernández que es que le fastidia pues mire no dirija su fastidio al partido popular dirija su fastidio al partido socialista porque señora sánchez

de verdad de verdad si la cosa no fuera tan seria sería para dar risa porque ustedes cada vez que pasan por el gobierno de españa en lo que son

hizo recortes porque era lo que más le apetecía de verdad hizo recortes porque estaban como estaban las arcas públicas porque el déficit era el que era

hasta que llegaron ustedes y vamos parecía ya de la familia la prima de riesgo o sea de verdad ustedes esquilmaron las pensiones ustedes esquilmaron

prometer y dar es gratis pero es que luego hay que pagar es que luego hay que pagar
y ustedes destruyeron empleo vamos o sea son unos campeones isiltasuna isiltasuna

saque usted una gráfica como esta de cuando gobernaba el señor zapatero sáquela que es así que es al revés que es que ustedes la tienen que invertir ustedes la tienen que invertir

de cómo dejan ustedes entonces oírle a usted hablar de empleo de verdad yo comprendo que
a ustedes les ha venido fenomenal porque ahora encima forman parte del gobierno vasco isiltasuna y aquí no se reclama aquí

les tengamos entretenidos pidiendo al gobierno de mariano rajoy pues a nosotros no nos exigen nada pues mire yo no he presentado enmienda porque iba a votar que no directamente

por dos cuestiones una porque constitucionalmente no es posible porque el tribunal constitucional así lo ha dicho y dos porque eso de que ustedes tengan la competencia sea sinónimo de que los problemas se van a solucionar perdóneme que lo dude y a las pruebas me remito

ahora mismo el grupo proponente en el que instábamos al gobierno vasco a presentar una planificación sobre el desarrollo de la ley de vivienda que permitiera

de la misma tanto como decía en las disposiciones reglamentarias como en el resto de cuestiones que tienen que ver con que efectivamente se desarrolle esa ley no era una propuestas novedosa por nuestra parte en sendas comisiones

propuestas similares en la primera comparecencia del consejero arriola también propusimos que nos parecía conveniente esa planificación dado que

decenas de decretos y de desarrollo normativo por hacer bien primero por el propio gobierno por una propia planificación del gobierno también y en segundo lugar por la organización y la planificación del trabajo de control de los grupos de oposición

de la ciudadanía porque creo que no podemos permitirnos tener una ley de vivienda razonable y avanzada

a desarrollar lo digo por justicia por transparencia y también por capacidad de control de la oposición que es nuestro trabajo en este caso en el parlamento vasco pero bueno respecto al acuerdo que hemos llegado entre los cuatro grupos

en torno a la creación del organismo único de vivienda que es un tema que está planteado

hemos llegado a este acuerdo y seguiremos trabajando en ello no nos corresponde a este grupo parlamentario ni a la oposición explicar la posición del gobierno sobre esto pero yo creo que por un tema también de trasparencia

en el calendario normativo quizás dentro de un tiempo sí pero bueno yo creo que merece la pena que el gobierno explique si en esta legislatura se va a poner eso en marcha lo que se quiere hacer eso si se quiere trasformar pero lo que no podemos hacer es hacer como que no está está en la ley respecto al alquiler que es donde

positiva de la ley no estábamos en la legislatura pasada en este parlamento pero bueno hacemos una valoración positiva evidentemente que tiene capacidad de mejora y nosotros tenemos

del cumplimiento también del derecho subjetivo a la vivienda tanto en la ley como en el acuerdo décimos que para dos mil veinte el cien por ciento de la promoción de vivienda tiene que ser de alquiler bueno pues nos tendremos que fiar tendremos que ir trabajando y generando confianza en que estos acuerdos se van

analizaremos con detalles los presupuestos de este año pero también los del diecinueve y los del veinte

realmente se ve la voluntad de cumplimiento de la ley de los acuerdos como decía en esa capacidad de mejora y de propuestas que tenemos para la ley

quedar corto sí que es verdad que protege y acompaña una serie de colectivos amplios pero es verdad que mucha gente trabajadora que igual no tiene

excesivamente buenas que tenemos que mejorar esa situación porque quedan fuera por los precios de alquiler desorbitados que tenemos en el mercado no se sostiene los salarios no se sostienen con los precios de alquiler ni siquiera de compra tampoco que hay en el mercado pensamos desde nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos que no nos podemos permitir que el sacrosanto mercado impida construir proyectos de vida de las personas creemos que podemos ir mucho más allá porque estamos viviendo en estos momentos en la clase trabajadora con unos salarios

de más de ochocientos euros de media creemos que eso es una situación totalmente insostenible y además que podríamos ir mucho más allá y

coto y limite a los alquileres privados sobre el registro de viviendas deshabitadas que está previsto en la ley vasca de vivienda que pensamos

de la acción legislativa es un tema de justicia y es un tema también

en el papel del tribunal constitucional en cómo está formado y lo que tarda en hacer una cosa o tarda en hacer otra pero bueno creemos que

hemos llegado a ese acuerdo en esta transacción no tenemos que esperar

y creemos que hay que desarrollar toda la normativa toda la capacidad administrativa del gobierno para que cuando esta situación

en marcha se pueda poner inmediatamente al día siguiente metafóricamente hablando pero bueno inmediatamente por tanto y por ir acabando

al que hemos llegado espero que a la mayor brevedad posible se empiecen a materializar los acuerdos que hemos llegado

específicos de este acuerdo parlamentario estaremos encima

que como muy tarde para la finalización de este periodo de sesiones estaría todo este tema desarrollado y que

ese calendario que decía y el mecanismo de registro de viviendas deshabitadas en eso estaremos en eso estaremos insistiendo

con el ánimo de trabajar y desarrollar esa ley de vivienda y también de mejorarla como decía al principio eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

también vamos a ser estrictos y aunque parezca mentira y seamos un grupo parlamentario que sostiene al gobierno creo que por

por nuestra manera de concebir estas cuestiones y porque esta ley es de autoría en buena parte nuestra pues

que cuando pongamos encima de la mesa y tengamos un debate sobre la posibilidad de crear o de no crear un organismo autónomo los argumentos que pongamos encima de la mesa

fundamento para que se dé ese paso o no porque lo haremos con convencimiento no por el hecho de estar en un gobierno vamos a ser

un marco muy apropiado para hacerlo dentro de lo que puede ser de función pública pero a mí me resulta significativo que cada vez que traemos cuestiones relativas a la ley de vivienda las cosas se aprueben por unanimidad y me parece importante porque fue una ley que contó con esa unanimidad con ese beneplácito

podemos decir que en buena medida sí existe una voluntad no solo de llegar a acuerdos sino de garantizar que esa ley

y se culmine por tanto creo que es muy de agradecer lo decía antes que todos estemos trabajando en esta cuestión con una visión de país

intentando dar pasos desde la firmeza desde el convencimiento cada cual evidentemente sin renunciar a sus postulados pero creo que con una visión de país que va a garantizar que este gobierno pueda seguir desarrollando normativamente esta ley y que de alguna manera tengamos una ley potente una ley que de alguna manera tenemos que conseguir que sea vanguardista que sea pionera y que verdaderamente nos ponga en la cabecera

teníamos muy claro que no era para diluir nuestra identidad que era para garantizar que políticas sociales políticas progresistas

materializar y teníamos muy claro que si un consejero socialista llevaba el departamento de vivienda eso iba a ser posible y que además nuestro concepto de política de vivienda de alquiler o del potenciamiento de las políticas de alquiler iban a recibir un importante impulso y creo que así está siendo y decía que

vanguardista y creo que lo está siendo a pesar de que todavía nos quede muchísimo desarrollo normativo por delante y nos quede muchísimo por hacer y si no me equivoco

varios destacados miembros del departamento del señor arriola comparecerán en el parlamento de las islas baleares para explicar precisamente

el alcance cómo se consiguió y todos los pormenores por qué porque ese parlamento está muy interesado en esa ley y en poder hacer algo parecido en las islas baleares y creo que es algo que nos debe hacer sentir orgullosos ser capaces

de exportar políticas sociales que sirvan a otras comunidades autónomas por tanto creo que estamos ante el principal reto de apuntalar un derecho social y creo que eso es

además lo está haciendo en cuestiones fundamentales como el decreto que va a garantizar el derecho subjetivo a una vivienda lo está haciendo además con generosidad no de manera unilateral sino incluso

compartiéndolo a través de un proceso participativo con colectivos con entidades con movimientos y creo que también es una cuestión a destacar y desde luego que tenemos muy claro que nosotros estamos para cumplir la ley y en este sentido ese segundo punto que vamos a aprobar hoy creo que es muy importante

creo que también es una cuestión de la que nos debemos de sentir satisfechos y orgullosos

desde luego que lamentamos que el tribunal constitucional todavía no se haya pronunciado al respecto de esos artículos que están suspendidos y yo desde aquí

soy un firme convencido en la necesidad de realizar

porque es una cuestión fundamental dentro de la ley y porque creo que este gobierno tiene que tener la oportunidad de ponerse a trabajar a la mayor brevedad posible en la creación de ese

por tanto necesitamos ese pronunciamiento pero tampoco nos vamos a parar y creo que en este sentido también está recogido el espíritu y los objetivos del gobierno en la medida en que de alguna manera el gobierno sí pone instrumentos y pone políticas en marcha que si bien no son lo que estaba concebido en la ley sí pueden ser de alguna manera algo complementario que nos permita ir avanzando como puede ser la potenciación de los programas de intermediación

en aplicar políticas de vivienda de alquiler y creo que les tenemos que ayudar tenemos que ayudar incluso y reforzar toda la política comunicativa

de lo que es concebido como viviendas turísticas tenga la oportunidad de conocer los beneficios que puede tener el tener una vivienda en alquiler por tanto creo que eso lo podemos hacer tenemos que trabajar intensamente para reforzar

no tengamos un informe o la resolución del tribunal constitucional podamos trabajar en estas cuestiones hablaba antes del presupuesto

va a quedar perfectamente reflejado y espero y deseo que en el próximo presupuesto tengamos un amplio

políticas de este tipo se puedan garantizar y se puedan sacar adelante por tanto para finalizar yo creo que es un día para estar

extiendo el agradecimiento a todos los grupos parlamentarios que han hecho posible que hoy esta transacción esté encima de la mesa y vaya a ser aprobada aunque el partido popular

enmienda me imagino que en algunas de las cuestiones que están reflejadas estará de acuerdo creo que es un día para estar contento porque hoy creo que volvemos a dar un paso firme

la garantía o en el hecho de poder garantizar derechos sociales para los ciudadanos y ciudadanas de este país como les he dicho creo que hoy hemos tenido altura de miras

y en este sentido espero y deseo que en lo sucesivo sigamos trabajando en esta línea porque eso sin duda alguna redundará en el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas

señora presidenta buenas tardes de nuevo a todos efectivamente como se establece en la iniciativa y aquí se ha dicho el dieciocho de junio de dos mil quince se aprobó la ley de vivienda y en dicha ley se recogían los puntos que

en la proposición no de ley original que era la creación de ese organismo autónomo dar preferencia

y la creación del registro de viviendas deshabitadas

criterios sobre esos puntos en ese momento y hoy sí que lo queremos

efectivamente creo que todos estamos de acuerdo tal y como ha dicho la representante del partido nacionalista vasco en esa necesidad de satisfacer la vivienda el derecho a la vivienda y que todos

y que puedan ejercer ese derecho reconocido constitucionalmente por eso siempre hemos defendido en esta cámara la necesidad de que euskadi contase con una ley de vivienda pero lo dijimos en ese momento y yo lo quiero reiterar hoy aquí que

no significaba que estuviesemos de acuerdo con cualquier ley de vivienda y no lo estábamos con la que se aprobó en ese momento por eso en su momento votamos en contra de la ley además ya dijimos entonces que esa ley nacía con inseguridad

el tribunal constitucional admitió un recurso a trámite suspendiendo parte de dicha ley

relativos a esa ley en relación a la creación del organismo autónomo nosotros ni estábamos de acuerdo en ese momento ni seguimos estándolo en esa necesidad de la creación del organismo autónomo

suficientes para desarrollar esas políticas como digo dirigidas a que todos los vascos puedan contar con una vivienda con relación a dedicar todos los recursos públicos al alquiler nosotros también expusimos nuestras salvedades en ese momento

porque es verdad que la demanda de alquiler cada vez es mayor y nosotros consideramos que en función de eso efectivamente debe darse prioridad a esa fórmula de acceso a una vivienda

no quiere decir que deba de ser la exclusiva nosotros ya lo dijimos en ese momento en el momento en el que se aprobó la ley y era que no se debieran excluir fórmulas distintas para satisfacer esa necesidad de vivienda además

lo que establecía esa ley es trasladar la acción de los poderes públicos al ámbito privado y trasladar cargas al ámbito privado y así existían en ese momento y siguen existiendo viviendas

se pretende trasladar la carga a los propietarios privados y penalizarles por no poner en alquiler dichos inmuebles por ello nosotros

porque en primer lugar considerábamos que chocaban con otros derechos que estaban constitucionalmente reconocidos y de esa manera poder dotar a la ley de seguridad jurídica

por ello todos los artículos relativos al alquiler forzoso de las viviendas deshabitadas y otros reguladores

a nuestro juicio y así luego después ha quedado patente de manera directa en ese estatuto del derecho de la propiedad cuya regulación compete exclusivamente al estado la regulación del canon de vivienda deshabitada el alquiler forzoso las expropiaciones forzosas chocaban con ese derecho y por lo tanto existían dudas de que

el tribunal constitucional y además de no estar de acuerdo porque se

con la constitución tampoco estábamos de acuerdo con la filosofía del mismo

coercitivas medidas positivas medidas que fomenten la puesta en el mercado de viviendas vacías y parte de esas enmiendas iban dirigidas en esa ley

que se debe seguir por parte del departamento de vivienda siempre lo hemos dicho creemos que es mucho mejor incentivar que penalizar que es mejor llevar a cabo medidas positivas que lleven y que empujen a los propietarios de los inmuebles a ponerlas en el mercado que no castigarlos por no hacerlo por eso no estábamos de acuerdo con ese registro y tal y como está perfilado en la ley ese registro va dirigido exclusivamente no a poder contar

que están vacías y de esa manera poder llevar a cabo una política de incentivos sino simplemente tener un instrumento que puedan permitir si se levanta la suspensión en su caso de esas medidas

estamos de acuerdo con ese registro que se pretende crear en cualquier caso evidentemente la ley se aprobó las leyes están para cumplirse y yo solicito que de la enmienda de transacción a la que se ha llegado los puntos uno dos y cinco si es posible se voten por una parte y los puntos tres y cuatro se voten por otra con respecto a los uno dos

a favor y con respecto a los tres y cuatro nos vamos a abstener porque aunque no estamos de acuerdo como he explicado con el contenido ni con ese registro evidentemente como decía la ley se aprobó la ley está para cumplirse y no nos vamos

era normal y creo que fueron coherentes con su manera de pensar y lo digo sinceramente

que le hicimos dos partidos de izquierdas que la trajimos a esta cámara y la conseguimos aprobar por tanto lo lógico es que ustedes no la apoyaran y le agradezco especialmente que una vez de que han asumido que esa ley está aprobada y que la tenemos ya encima de la mesa pues

para poder garantizar que se desarrolle en su totalidad y la podamos tener a pleno rendimiento

usted hablaba de inseguridad yo no creo que esta ley nació con inseguridad yo creo que esta ley nació sin complejos

de la mesa y creo que muchas veces cuando haces política desde la vanguardia y no desde la retaguardia

desde el tribunal constitucional pues igual no se toleraban muy bien pero bueno espero y deseo que en algún momento y a la mayor brevedad posible el tribunal constitucional entienda no solo la buena fe que tuvimos nosotros

concreto sino que más allá de eso de la necesidad que tenemos de crear ese registro de viviendas vacías como instrumento para facilitar esa política de alquiler en la que los socialistas creemos vehementemente

y ojalá lo tengamos cuanto antes usted hablaba de políticas coercitivas no

se castiga cuando se intenta especular y cuando una persona tiene viviendas

de verdad se lo digo lo sentirá como un castigo pero no creo que sea un castigo

y con el que nacerán las políticas que consiguientemente este gobierno sea capaz de sacar adelante nosotros queríamos incentivar el alquiler y entendemos que cuando hay gente que cuando hay propietarios que tienen viviendas vacías

entiendo que cuando el ánimo es especulativo eso

concebido con un ánimo constructivo y desde un espíritu

afortunadamente se está exportando a otros parlamentos a otras cámaras y creo que es algo que nos debe de satisfacer enormemente

aprobatzeko por qué porque eso también va a facilitar que dentro de nuestro concepto dentro del camino del recorrido y del rumbo que el departamento del señor arriola está poniendo se potencia la política de alquiler y como decía y enlazo con el tema del registro de vivienda

ni tan siquiera quizá de trabajar en balde en la medida en que sin tener unos criterios definidos podamos comenzar a trabajar en ciertas cuestiones que después no sean o no vayan en la medida del pronunciamiento del tribunal

políticas que permitan impulsar el alquiler de viviendas vacías y como decía seguir dando pasos firmemente para que esta ley

erantzun txiki bat emateko yo entiendo que cuando el

algunos artículos de la ley de vivienda y concretamente el concepto de la vivienda deshabitada entiendo que

a partir de ahí entiendo que el concepto de vivienda deshabitada un concepto una definición que veníamos demandando desde

aclara y facilita el poder desarrollar políticas de vivienda en este caso y creo que en cualquier caso el registro de vivienda vacía o deshabitada es necesario

los grupos de esta cámara sobre cuáles son las medidas que se deben de adoptar desde las instituciones para el fomento

yo no voy a ocultar tampoco cuál fue la posición de mi grupo y mi partido en la tramitación y aprobación de esta ley

que podrá darnos la información que quizá necesitemos para poner en marcha políticas y medidas

incentivar me gusta más que castigar eskerrik asko

desde el escaño y simplemente para señalar

que se oponían a la ley como el partido nacionalista vasco hombre a mí eso de que es una ley

lo dije cuando se debatió la ley que la haga un partido de izquierdas ya inmediatamente

lleva la bonanza de la ley y nosotros no estamos de acuerdo con ello en absoluto y se ha dicho también que fue una ley sin complejos y con valor

lo dije entonces y lo sigo manteniendo ahora se decía en esa ley parecía que a partir de esa ley todos los vascos y todas las vascas que lo necesitasen iban a tener una vivienda a su disposición y se está viendo que no es así porque fundamentalmente esa vivienda a través de cómo se está cubriendo esa necesidad vivienda

antes de dicha ley con lo cual como digo hubo mucho bombo en esa ley y

los mandatos de la constitución pues creo que no se puede alegar pero en cualquier caso como bien se ha dicho aquí la ley se aprobó

se aprobó la ley sé acatarla o si no adoptar las

que el bienestar sea una realidad para todas y todos que todas y todos independientemente de nuestro punto de partida podamos aspirar a vivir mejor y que en el camino

la red la solidaridad y la confianza en nuestras capacidades el sistema vasco de servicios sociales junto con el sistema sanitario y el sistema educativo

para que el bienestar y el vivir mejor sean una aspiración posible para todas las personas para elkarrekin podemos estos tres pilares son tema central de agenda y hoy traemos propuestas de mejora del sistema vasco de servicio sociales la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre es un hito en el avance hacia un sistema vasco

a los servicios sociales los posteriores decretos de cartera el plan estratégico el mapa de servicios sociales completan un marco normativo ambicioso y de avanzada pero existen algunas debilidades y riesgos que pueden obstaculizar o dificultar se desarrolle en la profundidad que el tema requiere creemos como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que la legislación que regula es positiva pero que corre el riesgo si no

y para proyectar propuestas de mejora hemos tomado como referencia entre otros elementos el informe extraordinario de la situación de los servicios sociales del ararteko que sabemos

un informe cuestionado pero no por ello deja de contener cosas que son de utilidad para afianzar nuestro trabajo además queremos aprovechar que estamos aquí para reconocer el trabajo del ararteko en sus informes extraordinarios y ordinarios porque entendemos que son un marco importante que nos ayuda y desde luego a caminar en nuestro trabajo parlamentario una de las debilidades que señala este informe del ararteko es la información disponible en el ámbito

del desarrollo de la normativa prestando unos servicios sociales más ajustados a las necesidades de las personas la cartera de servicios sociales establece que al gobierno vasco le corresponde entre otras acciones

dispone entre otros muchos del instrumento denominado sistema vasco de información el sistema vasco de información sobre servicios sociales a día de hoy

necesarios para tener un conocimiento actualizado y elementos para realizar

es importante evaluar pero también como hoy llegar a consensos que nos permitan seguir avanzando en este sentido presentamos una enmienda transaccionada por todos los grupos que tienen representación en esta cámara en la que señalamos tres ámbitos de actuación en primer lugar

que sirven para conocer la evolución y necesidades del mismo así como las debilidades detectadas y márgenes de mejora del sistema como pueden ser la carencia de indicadores homogéneos el desfase temporal

obtener información detallada sobre todas las prestaciones para que las administraciones competentes en la planificación

y hacer una previsión de las necesidades que tiene el sistema en segundo lugar el parlamento insta al gobierno a constituir

y la propuesta de medidas de mejora de las debilidades detectadas en relación al sistema de información y sobre todo que trabajen por la interoperabilidad de registros indicadores y parámetros que van sin duda

además de esto se insta a que se cuente con el órgano estadístico del propio departamento así como con el ararteko y por último al desarrollo de un sistema homogéneo de registros indicadores y parámetros basados en la interoperabilidad para lo cual consideramos fundamental que se estudie la viabilidad de utilizar tecnologías de software libre como una manera de apostar por herramientas que permitan garantizar

agradecer de nuevo a todos los grupos firmantes la disponibilidad para transar esta propuesta y para llegar a un acuerdo ya ven que he sido breve espero que todas

gracias señora presidenta señora

compañeras parlamentarias como diría el señor uria

adecuada efectivamente hemos llegado a un acuerdo akordio batera heldu gara

emango diogu como decía los dos puntos que contemplábamos en nuestra enmienda de totalidad aparecen recogidos en la enmienda de transacción que hemos suscrito con el resto de grupos con representación en esta cámara por lo tanto en ese sentido satisfacción creemos que es importante también hacerse eco de las propias recomendaciones que en su informe

situación de los servicios sociales municipales de la comunidad autónoma del país vasco señalaba y algunas o las más importantes desde luego están recogidas en este

vamos a apoyar esta enmienda de transacción esperemos que más pronto que tarde el gobierno vasco

a este acuerdo y con tal cumplimiento también con los estudios que se van a poner en marcha en relación a las debilidades del sistema también al grupo

indicadores en el sistema vasco de servicios sociales

se puedan poner en marcha implantar y que desde luego que al final todos los ciudadanos salgamos beneficiados de dichas mejoras por lo tanto no tengo nada más que añadir eta eskerri asko

arartekoak esandako horietaz gain hauek ere hor ditugu en definitiva debido a su trayectoria y a sus ritmos y a sus características particulares el sistema

todavía no tiene un sistema unificado de información que contribuya a mejorar las labores de planificación y evaluación o su conocimiento por parte de la ciudadanía

de observatorios sistemas de información que ofrecen datos indicadores y tal y se hacen muy buenos estudios

no tenemos un sistema conjunto y homogéneo para las recogidas de información eta nik gaur hemen argi utzi nahiko nukeena da ez baldin badaukagu

tenemos mucho que predicar en el ámbito de lo social en lo referido al sistema de recogida

que es conocida nuestra preocupación por el desarrollo y los ritmos que tiene

y también pues que nos preocupa mucho una cosa que hemos reiterado en muchas ocasiones y es la falta de liderazgo del gobierno vasco en todo este desarrollo y para nosotros esto que pasa con la recogida de información no es más que otro elemento que confirma un poco nuestra tesis nueve años

que nos permita una recogida de información y de explotación

resulta difícil de entender si hubiera sido una prioridad porqué no lo tenemos pero bueno como hay que mirar hacia delante

recogido en la ley dos mil ocho de cinco de diciembre reguló y ordinó todo el sistema vasco de servicios sociales de carácter universal y el deber de coordinar

establecía el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales a todas las personas titulares del derecho que cumplan los requisitos de acceso al mismo toca desde el gobierno vasco y del resto de instituciones diputaciones y ayuntamientos

sin que se produzcan desequilibrios o intentando evitar sus desequilibrios la crisis económica ha aumentado las posibilidades y las causas para que los ciudadanos puedan caer en la exclusión social

estadística de servicios sociales en la comunidad autónoma de euskadi nos ofrece una abundante información ya mejorado en los últimos

y se han efectuado además diversos estudios en torno a los sistemas de servicios sociales

y así como las necesidades del mismo es decir poder detectar cuáles son sus luces y sus sombras

efectuar las correcciones necesarias entre ellos hay que destacar el informe del ararteko sobre la situación de servicios sociales municipales en la comunidad autónoma

donde ponía de manifiesto la existencia de una carencia de información suficiente por la existencia de un desfase de dos años en la información recibida así como diferentes dificultades de

cuestiones y además ponía de manifiesto la ausencia de un marco organizativo común que incluyera registros indicadores

de base y al escaso desarrollo que ha tenido el sistema de información del sistema vasco de servicios sociales es por ello

la enmienda transaccional que hoy firmamos por unanimidad todos los grupos de esta cámara va dirigida a buscar la corrección de una serie de cuestiones precisamente para mejorar cómo en el tercer punto de la enmienda

indicadores y parámetros basados en la interoperatibidad para la

y diputaciones y además también para constituir un grupo de trabajo dentro del consejo vasco de servicios sociales

de mejora de ese sistema de información y además también indica quiénes pueden formar parte de ese grupo todas estas medidas nos van a permitir mejorar el sistema de información del sistema vasco servicios sociales y nosotros consideramos que es positivo por eso creemos que es bueno la enmienda transaccional a la que hemos llegado hoy y desde luego pues agradecer que todos los grupos el esfuerzo hecho por todos los grupos que hemos conseguido una unanimidad en la enmienda que hoy vamos

hiru herrialde historikoetan eta udaletxeetan respecto al informe del ararteko titulado la situación de los servicios sociales municipales aquí sí que discrepamos

ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con algunas de dichas afirmaciones y conclusiones que incluso trasladamos al propio ararteko cuando presentó el informe en comisión

los datos están desfasados para cuando se presenta

lo cual generó cuando menos malestar en eudel porque además dichas conclusiones no habían sido compartidas previamente con los ayuntamientos por lo tanto

de una situación superada para cuando se presentó creo que es un dato importante a tener en cuenta dicho esto

todavía hemos de continuar coordinando y mejorando el sistema a fin de dar el mejor y más homogéneo servicio

es imprescindible poner en valor el alto grado de consenso alcanzado en el desarrollo del sistema vasco de servicios sociales aunque sea más lento de lo que nos gustaría

amplios cuando no unánimes nos parece primordial porque dota al sistema de solidez estabilidad y seguridad para la ciudadanía hau esanda egia da

era koordinatuan elkarlanean aritzea funtsezkoa da sistemaren ahultasunak gainditzeko ere creemos que a día de hoy es importante hablar de interoperabilidad

y para ello instamos al gobierno a constituir un grupo de trabajo

indicadores y parámetros lo más homogéneos posibles que permitan la interoperabilidad de datos es ese el sentido de los puntos segundo y tercero de la enmienda transaccional que hemos presentando y firmado todos los grupos nos congratulamos una vez más del acuerdo alcanzado en esta materia porque sinceramente creemos que para seguir avanzando aunque sea despacio es primordial
hacerlo de forma conjunta y consensuada dotando de estabilidad y solidez al sistema para que no se den pasos atrás besterik ez eskerrik asko arregi andrea

muchas gracias presidenta consejeras señoras y señores parlamentarios

el objetivo de la iniciativa de la proposición no de ley pues será

y sobre todo hacerlo como lo hicimos en el mes de junio

cuatro cuestiones el primer lugar junio y julio y además suele ser habitual meses donde los accidentes con ciclistas y con cicloturistas implicados son más intensos que otros meses del año generalmente en la práctica

y en ese sentido también fueron muy alarmantes y muy preocupantes algunas de las situaciones que se vivieron en diferentes carreteras de españa del estado español

de estar de recibir a una asociación de ciclistas y de cicloturistas

cuestiones que tenían que ver con muchas ámbitos con el propio de la práctica del ciclismo del cicloturismo la situación

en esas fechas la situación que pasaba en las carreteras también

año se incrementa se incrementa la venta de bicicletas con el fin de practicar el ciclismo de carretera ciclismo de montaña

al trabajo a la universidad a las escuelas y a los colegios y en ese sentido

también eso va aumentando y también nos permitió ese ámbito

venta y el incremento de personas participando en el

en relación con el ciclismo pues que daba una serie de que hablaba de elaborar

una guía que defina medidas para garantizar la seguridad y protección de los ciclistas de difundir

utilizando los medios más adecuados en cada caso las conclusiones y las medidas de la citada guía campañas de sensibilización

de los ciclistas y deportistas es decir se ponía en valor hace cuatro años ya lógicamente pues lo que estamos ahora es tratando de volver a hacer una evaluación

el objeto de la iniciativa está ahí en relación con una evaluación y poder saber cómo estamos y qué medidas se pueden implementar porque las hay es decir las hay las hemos podido ver y me referiré brevemente a las mismas

con la transacción también tenemos que decir unido a estas consideraciones en relación con traer esta proposición esta iniciativa aquí de la oportunidad

pues el hecho de que el país vasco precisamente también es la práctica está muy arraigada la práctica del ciclismo históricamente

no tiene licencias federativas sino que lo practica pues normalmente sin licencia pero bueno es una práctica arraigada en euskadi especialmente en gipuzkoa que donde yo sabemos de la afición

en gipuzkoa especialmente y además en gipuzkoa con algunos problemas añadidos en relación con algunas carreteras y tramos y accesos donde practica mucho ciclismo y hay mucho peligro eso

asociaciones lo ponen de manifiesto permanentemente nosotros habíamos

vuelvo a decir que durante las semanas aquellas previas a la presentación de la iniciativa se habían producido y fue alarmante ver los telediarios de los días un número muy elevado de accidentes donde las víctimas habían sido ciclistas

por vehículos en distintas carreteras las circunstancias y hechos han vuelto a poner de manifiesto dos cuestiones

la irresponsabilidad de muchos conductores y conductoras de vehículos en carretera en vías y la

vulnerabilidad de los ciclistas en las mismas pero también habría que sumar otros factores como la impericia de muchos ciclistas o la inseguridad de ellos mismos en relación con sus primeros contactos con la carretera con las bicicletas o también el estado de algunos tramos de algunas carreteras de algunas vías

llaman la atención en relación con lo que estaba pasando y podíamos ponerlo de manifiesto yo creo que en ese sentido habíamos presentado esa iniciativa nosotros pedíamos en la iniciativa un informe sobre la situación actual de seguridad en las carreteras vías en relación con la práctica del ciclismo cicloturismo y el uso como transporte personal como decía antes o profesional o deportivo efectivamente en determinados viales y carreteras

actualmente existentes las propuestas y medidas de mejora de las vías y las recomendaciones en vigor como consecuencia del mayor uso de la bicicleta eso es constatable y es objetivo y campañas a desarrollar por el gobierno vasco de cara a la sensibilización de la seguridad de conductores

de cualquier tipo nosotros hablábamos de quién pudiera efectuar ese

departamento de seguridad del gobierno vasco en coordinación con deportes y con las instituciones locales y forales pero bueno en cualquier caso la propuesta

de los grupos que apoyan al gobierno y de la enmienda de bildu

iniciativa era precisamente por eso esa necesidad de hacer ese control que ya

en colaboración con la federación de ciclismo y que a partir de esa evaluación

mantenemos la nuestra pero votaremos a favor de la enmienda

en ese sentido de lo que comentábamos como práctica del ciclismo también hemos visto cómo la verdad es que las sugerencias que se hacen desde muchos ámbitos pues ahí están lo hemos visto además

iniciativa cómo son abundantísimos las nuevas

los sucesos que ocurrieron y cómo instituciones y ámbitos como la dirección general de tráfico desde luego pero race o revistas especializadas en

pero también en el automovilismo como factor hemos visto

federaciones deportivas han hecho un auténtico esfuerzo en dar

y medidas de seguridad en relación con la práctica del ciclismo y del cicloturismo incluso en algún sitio hablaban de los dispositivos en relación con la bicicleta del casco luminoso el separador lateral

innovaciones que también se tendrán que analizar seguramente el detector de peligro la bicicleta luminosa

el lector de carretera la pulsera intermitente los intermitentes ciclistas el candado luminoso hay una serie de cuestiones que se han puesto de manifiesto y que están ahí o sea que en ese sentido yo no tengo nada más que decir

esta iniciativa con el fin de llamar la atención con el fin de que se trabajara en un momento especialmente delicado vuelvo a decir con mucha más gente sobre bicicletas en nuestras carreteras porque eso es constatable e identificable

como valor por un lado de práctica deportiva pero como riesgo también

para solventar los problemas que seguramente se seguirán presentando muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta quevedo dijo que no vive el que no vive seguro y efectivamente la seguridad es parte esencial de la libertad y de la integridad de todas las personas

de la vida en el que la seguridad está permanentemente agredida probablemente por malas conductas por excesos y

la seguridad final ni la seguridad completa sino que permanentemente

y hay que mejorarla el señor barrio nos propone que lo hagamos ha hecho las explicaciones correctamente por lo tanto estamos muy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho y también con

que cualquier otra cosa que es el número de accidentes en crecimiento que se han ido produciendo en las carreteras vascas

por lo tanto si esos datos que son

de una realidad pero que no son el principio es decir cuando hay accidentes y además algunos de ellos con consecuencia

y muchas más dificultades a la hora de practicar el ciclismo que las que realmente reflejan el número de accidentes y por lo tanto estar vigilante tratar de resolver todos los problemas que se están creando al respecto y también de incorporar aquellos avances en la seguridad

tiene que ser permanentemente alertada y revisada en este parlamento como lo ha hecho el señor barrio la única diferencia por decirlo así que creo que tampoco por sus propias explicaciones y su adhesión a lo que es la enmienda transaccional

en un colaboración interinstitucional entre los ayuntamientos diputaciones y gobierno vasco

a mi modo de ver de una forma mucho más directa y mucho más rápida que es entre la dirección de deportes del gobierno vasco y la federación de ciclistas del país vasco que además

implicados y afectados sino muy interesados con toda seguridad en poder participar de ello y luego además con la implementación del propio departamento de seguridad llevando esas conclusiones al propio departamento con el fin de que se pueda tanto en la parte formativa en la parte educativa en la parte didáctica como en las medidas concretas de seguridad se pueda abordar esto se pueda hacer una divulgación se pueda hacer un seguimiento

en fin yo creo que en ese objetivo estamos todos lo compartimos todos y en este pleno de hoy con seis puntos tan unitarios en el que todo ha salido prácticamente por unanimidad

así creemos que en primer lugar hay que poner en valor el trabajo realizado por no remontarnos a hace demasiados años ya en verano de dos mil trece

para promover y mejorar la protección de los ciclistas la primera precaución y respeto todos compartimos la carretera

como he dicho de este parlamento y su objetivo es el de informar sobre los usos y

por parte de peatones ciclistas y también conductores de automóviles la segunda titulada esto va sobre ruedas está pensada para promover el uso seguro de la bicicleta entre familias y además se reparte pues en los diferentes centros de salud de euskadi y así como también en los diferentes centros escolares

tenemos por un lado el de mejorar la seguridad vial de los ciclistas y del resto de personas usuarias de las vías y en segundo lugar

no debemos olvidar el compromiso que este gobierno tiene con las personas en este caso con las personas usuarias de las vías y de carreteras vascas

el colectivo ciclista se puede sentir identificado en ellos y cuya seguridad

otro de los ámbitos importantes que se menciona también en la proposición no de ley del señor barrio es el tema de la accidentalidad en este sentido creemos que también el gobierno viene dando pasos en los últimos años en concreto a través de la dirección de tráfico y no en vano entre finales de dos mil trece y principios de dos mil catorce además de otros años

y monográficos que ahondan en el tema en estos informes el objetivo es estudiar las características de los diferentes tipos de accidentes de forma que después se puedan implementar las mejores soluciones posibles teniendo en cuenta las características de este tipo de sucesos asimismo cabe recordar también que

destinados a todas las personas usuarias de las vías y por supuesto también a las personas usuarias de las vías con bicicleta sin ir más lejos este último verano se promovió una actualización de la guía precaución y respeto dirigida a personas conductoras tanto de automóviles como

que hemos comentado de sensibilización pero no solo eso ya que el departamento de seguridad colabora activamente con el colectivo de ciclistas y cicloturistas de euskadi

anualmente y periódicamente técnicos de la ertzaintza y también del departamento de tráfico del gobierno vasco se reúnen con

anual de pruebas ciclistas y también para revisar los requisitos de seguridad

y también poner en valor una herramienta que se puso en marcha en dos mil quince que está actualmente en vigor y que lo estará hasta dos mil veinte que no es otra que el plan estratégico de seguridad vial y movilidad

un plan que por primera vez en dos mil quince fijaba objetivos generales y metas estratégicas concretas cuantificables además que implicaban un mayor compromiso por parte del gobierno

por recordarlas estas son proteger a los colectivos vulnerables como puede ser el colectivo ciclista

corregir comportamientos inadecuados y favorecer la movilidad segura y sostenible en entornos urbanos que cada día son más complejos así por ejemplo encontramos objetivos concretos como el mantenimiento al cero del número de fallecidos

de heridos graves en entornos urbanos o también el de reducir un setenta y cinco por ciento

para todo ello son fundamentales la educación vial la investigación del tráfico y la seguridad vial la gestión del tráfico la vigilancia y el control y también un modelo de gestión avanzado como el que se está adoptado por parte del gobierno también relacionado con la accidentalidad y ya lo han comentado

se han mencionado una serie de datos que solicitó el señor barrio a principios de julio sobre accidentalidad entre dos mil quince y dos mil diecisiete y en este sentido desde nuestro grupo creemos que hay que poner en valor

aunque sí se han producido heridos heridos graves además y creemos que hay que seguir trabajando porque esa cifra continúe reduciéndose

del departamento de seguridad y para ello hay que trabajar conjuntamente para lograrlo todo esto es importante como también lo es la comunicación y la concienciación en este sentido el departamento de seguridad del gobierno vasco a través de las guías documentos y demás información que he mencionado a lo largo de mi intervención pues bueno está realizando una labor importante en este ámbito ya sea a través del trabajo en centros escolares como en otros ámbitos educacionales

igualmente importante es la transversalidad y el trabajo en común no podemos olvidar que en este tema confluyen una serie de intereses por parte también competencias las que tienen las diputaciones en sus vías

y en este sentido creemos que hay que hacer un esfuerzo conjunto en el que cada una de las instituciones realice su labor en el marco de sus competencias y siempre con el gobierno vasco persiguiendo un objetivo común que es el de mejorar la seguridad vial por todo ello es por lo que nuestro grupo va a apoyar la enmienda transaccional lograda por el partido socialista y con euskal herria bildu

instamos a las instituciones competentes ayuntamientos diputaciones y gobierno a continuar trabajando en mejorar la seguridad de las personas usuarias de las carreteras vascas así como también a realizar una evaluación de las medidas adoptadas hasta ahora

trasladen al departamento de seguridad y este las analice y las tenga en cuenta para actualizar la retahíla de guías informes y demás información disponible hasta ahora y en ese sentido pues bueno creemos que es importante el consenso al que se ha llegado hoy

intentando ampliar un poco el campo

porque si bien es cierto que los atropellos de ciclistas en vías urbanas e interurbanas generan conmoción y preocupación

y un apoyo social evidente hacia las víctimas es posible que la comprensión del fenómeno

que si nos fijásemos en cuál es la percepción que tenemos por ejemplo del uso de la bicicleta en euskadi pues pensaríamos que fundamentalmente es un uso de fin de semana para actividades deportivas o de ocio

y si nos ponemos a discutir sobre ciclistas pues acabaremos hablando de marino y de gorospe

pero es una percepción como digo parcial parcial y mediatizada la bicicleta es ante todo un vehículo y así lo define el código de circulación es un vehículo

y además es el vehículo más frágil de los que circulan por las vías públicas por lo tanto la vida humana que circula en ese vehículo es la más vulnerable

visto desde ese punto de vista bastaría con decir que hay que aplicar las normas del código de la circulación y hacerlo cumplir y eso es cierto y es importante pero no es lo único

si nos salimos de ese fin de semana donde tenemos a los ciclistas haciendo deporte y cogemos esa misma bicicleta para ir por esa misma carretera en un día laborable la posibilidad de que un camión o una furgoneta de reparto o un automóvil con prisas porque es un día laborable y llega tarde al trabajo nos atropelle o incluso

es mucho mayor que en el fin de semana por lo tanto

aquí este tema y se lo agradezco desde el cariño personal que le tengo

ahora mismo los ciclistas los y las ciclistas tienen un problema grave con la actitud que ha tenido el partido popular a nivel estatal en la aprobación de ciertas leyes que les han incorporado problemas que no tenían antes por ejemplo la reforma del código penal ha despenalizado las faltas por imprudencia

atropellar con resultado de muerte a un ciclista solo supone cuatro años de cárcel y yo sé que el partido popular y otros grupos están trabajando para subsanar ese error ese tremendo error

pero a día de hoy es lo que tenemos también sucede que el partido popular por ejemplo ha modificado la normativa de valoración y perjuicios ocasionados en accidentes de tráfico fundamentalmente para beneficiar a las empresas aseguradoras pero indirectamente esto ha perjudicado a las personas ciclistas por qué porque por ejemplo se han elevado los costes de peritación de las aseguradoras y ahora mismo hacer una peritación forense de una persona atropellada

y también litigar contra una aseguradora por parte de un particular o de una particular en este caso la ciclista atropellada implica

del juicio si lo pierdes lo cual hace que muchos ciclistas atropellados no vayan a juicio precisamente para evitar eso entonces lo que tenemos es que ahora mismo atropellar a una persona ciclista es muy barato desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de las indemnizaciones que tienen que pagar las aseguradoras yo entiendo que esto

de mi intervención pretende ampliar el campo del problema pero además los ciclistas los y las ciclistas tienen muchos otros problemas en este país de arcenes inexistentes o de arcenes sucios que obligan a que el ciclista o la ciclista tenga que salirse hacia la calzada para evitar obstáculos que a veces

de falta de respeto como ya se ha dicho por parte de otros vehículos pero tienen también un problema de que no hay bidegorris o de que en ocasiones los bidegorris se ponen en las zonas de paseo con lo cual al final los peatones acaban ocupando el bidegorri y los peatones todavía son más vulnerables que los ciclistas

en muchos medios de transporte no se pueden cargar las bicicletas y eso ocasiona que haya que utilizar en ocasiones se tengan que utilizar las vías interurbanas

en cualquier caso sí vamos a apoyar la enmienda transaccional que se ha presentado por parte de otros grupos y vamos a dar un apoyo crítico

del espíritu de esa enmienda no se detrae que la bicicleta como he dicho al principio es un medio de transporte es ante todo un medio de transporte todas las soluciones que se apliquen serán parciales pero además la bicicleta no solo un medio de transporte sino que es el medio de transporte más sostenible y más saludable

es el que menos espacio ocupa y es el que más contribuye a luchar contra el cambio climático por lo tanto apoyar a la bicicleta no solamente implicaría retirar otros vehículos de la vía pública sino que ayudaría a pacificar el tráfico

en la enmienda transaccional se mencionan tres medidas que nos parecen especialmente importantes una es favorecer la convivencia entre los usuarios de las vías cierto pero basándonos en el principio de la vulnerabilidad hay que proteger más a aquellos vehículos que son más vulnerables y por lo tanto la bicicleta tiene que ser

de protección prioritaria en segundo lugar se dice que hay que adaptar las vías a los nuevos usos cierto pero teniendo en cuenta una cuestión la bicicleta ha venido para quedarse no es una cuestión anecdótica no es una cuestión solamente de deporte es un medio de transporte que cada vez va a ser más utilizado

hay que realizar campañas de sensibilización también es cierto de acuerdo

las normas de circulación pero también de los agentes de tráfico de los y las agentes de tráfico

son precisamente esos agentes de tráfico quienes no consideran la bicicleta como un medio de transporte más quienes no lo incluyen dentro del reglamento de circulación y por lo tanto flaco favor
hacen a la pacificación de las vías y a la seguridad de los propios ciclistas nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

barrio jauna zurea da hitza sí gracias
desde el escaño con su permiso señora presidenta brevísimamente para decirle al señor becerra también desde el cariño que

aprovechado el momento este pues para hacer

lo habitual pero yo tengo que decirle que precisamente en esas claves que el pasado mayo

el comité de seguridad vial de la dirección general de tráfico tuvo una reunión especial además para tratar este tema y la incidencia

los conductores y de ahí salieron muchas medidas

que implementará la dirección general de tráfico otras que se acordarán

con las comunidades autónomas y otras que ya el propio gobierno está tomando en relación con actuaciones sobre los causantes de la accidentabilidad incrementando además procedimientos sancionadores en relación con esa cuestión yo creo que eso que pudo ser un error parlamentario que lógicamente se está subsanando y se está analizando y se corregirá convenientemente además se están

neutralización de esas conductas irresponsables delictivas en la carretera y en especial con la reincidencia

o quienes son consumidores de alcohol y drogas etcétera etcétera yo creo que ahí se está tratando y esa reunión precisamente trataba de fortalecer

de sanción al conductor irresponsable y al causante de atropellos o de accidentes donde se involucren a ciclistas y lógicamente la protección de esa seguridad pero
yo le tengo que decir también al señor becerra que ya se está trabajando en esa cuestión muchas gracias eskerrik asko barrio jauna beste norbaitek ez ezta